se debería de vacunar como si no hubiera un mañana behin eta berriro errepikatzen digute bat gatoz espresio horrekin baina oso

lehenestea eta honekin ez dugu esan nahi bigarren dosia jarri behar ez denik pero hay que priorizar la primera dosis inocular según vayan llegando

en estos momentos guardar vacunas no tiene mucho sentido no por lo menos en la cantidad en la que se guardan

y cuando ha habido algún problema se ha solventado con bastante rapidez

puede guardar algunas poquitas pero no en la cantidad

es hora de proteger a las personas y sobretodo proteger a las más vulnerables por lo que es hora de acelerar de acelerar y priorizar la vacunación

y moderna ya que son las que ese utilizan para vacunar a las personas más vulnerables

por nuestro grupo la llegada de la vacunación se ha convertido

global mucho más allá desde luego de euskadi la meta es acelerar la curva de vacunación para inmunizar a millónes de personas en tiempo récord un desafío científico

nunca antes realizado a escala mundial es verdad nosotros en esto estamos de acuerdo que la velocidad de vacunación es un elemento importante muy importante para garantizar cuanto antes esa inmunidad de grupo

esté protegida nosotros estamos de acuerdo en esto y así además lo hemos venido

diferentes comisiones de salud que vamos realizando todas las semanas en este parlamento

que hay que decir que con el paso de las semanas de los meses ya se ha demostrado que el mayor cuello de botella de la vacunación en españa son las dosis recibidas y nosotros aquí tenemos que señalar a las multinacionales farmacéuticas nos parece que no se puede hablar de esto sin al menos señalar esta cuestión

los contratos de compras de vacunas no podemos hablar de esta cuestión sin mencionarlo la unión europea ha mostrado su gran debilidad a la hora de defender

corporaciones farmacéuticas una vez más es el mercado amigos ayer conocíamos el último capítulo con los treinta millónes de dosis que astrazeneca tenía en italia destinados

casi seguro que a reino unido cuando ha incumplido sus acuerdos de entrega de vacunas con la unión europea sabemos que lo que está primando de nuevo

en la investigación y desarrollo de las vacunas que estamos recibiendo se ha invertido una gran cantidad de dinero público sin embargo a la hora de acceder a ellas para poder vacunar a la población no somos más que un cliente en un mercado donde la demanda

la oferta y esto hay que decirlo y hay que denunciarlo y nosotros lo denunciamos previamente al debate sobre la campaña de vacunación en euskadi porque está directamente relacionado con los ritmos de vacunación nosotros como decía antes reconocemos que el ritmo de vacunación es una cuestión muy importante y hemos venido reclamando lo habrán escuchado las

que acuden a la comisión de salud la mayor celeridad dentro de lo posible porque aquí sí que tenemos pues una diferencia con el primer punto de la iniciativa del grupo proponente del grupo

eh bildu si bien conocemos que en la comunidad científica se está dando ese debate sobre la conveniencia de inocular la primera dosis también en este tipo de vacunas

de esa segunda dosis sabemos que se está dando ese debate pero nosotros pensamos que en estos momentos y hasta que la comunidad científica

definitivamente un cambio de posición hasta que los organismos de supervisión

de salud no cambien el criterio hasta que no se modifiquen las instrucciones relativas a las vacunas nos parece que lo prudente es seguir las recomendaciones que con esas vacunas o que a esas vacunas vienen aparejadas

de la segunda vacuna pero pensamos también que en euskadi ha habido una mala planificación esto es algo que también nos han escuchado y que en más de una ocasión el gobierno vasco se ha escudado

en el suministro de vacunas para justificar lo que ha sido una mala planificación de la campaña de vacunación y que ha repercutido también en un ritmo de vacunación

más lento que en otras comunidades del estado y que nosotros no quisiéramos convertir esto carrera entre comunidades por la velocidad de vacunación pero sí que nos demuestra que con los mismos suministros de vacunas podíamos haber realizado otro tipo de campaña de vacunación más acelerada si bien

de la campaña de vacunación porque como digo la reserva de las vacunas arn si está planificada y lo que busca es garantizar esa segunda dosis

que no siempre han cuadrado si los números cuadran y la reserva estratégica es para planificar y garantizar esa segunda dosis nosotros mientras las indicaciones

no lo vamos a impugnar ahora bien hemos venido denunciando que la planificación de la campaña

mala ha sido una campaña de vacunación a trompicones con noticias y sobresaltos prácticamente cada semana ha generado muchos problemas y muchas disfunciones hay colectivos concretos que han sido vacunados

los criterios de vulnerabilidad porque si recordamos cuando empezó la campaña de vacunación la gran frase era primero

pero ha habido muchos fallos concretos en colectivos específicos y eso ha sido por una mala planificación por una insuficiente planificación respecto a grupos

y no todo puede justificarse con las recibidas que sabemos que influyen y así también lo hemos reconocido pero ha habido demasiados fallos también respecto a las vacunas inoculadas a los profesionales que trabajan en contacto estrecho con pacientes covid

denunciado en más de una ocasión finalmente ya se llevó a cabo la vacunación de los profesionales de ambulancias

pleno no tenía ningún sentido que tuviéramos a profesionales

con pacientes covid vacunados y a trabajadoras y trabajadores de ambulancias con contacto directo con pacientes covid como decíamos además en ámbitos

que se llaman hostiles sin vacunar

sí ha habido una improvisación y en eso nosotros desde luego sí que nos vamos a mantener y sobre todo pensamos y así lo expresábamos también ayer en la comisión de salud

que estamos en un buen momento para replanificar nuestra iniciativa

que tiene puntos en común con la parte de la iniciativa del grupo proponente relativa a los siguientes puntos a partir del primero

va en esta línea para instar al gobierno a una mejor planificación a una planificación más detallada que como en más de una ocasión hemos dicho y yo tampoco me voy a cansar de defender

sabemos que depende de muchos factores externos uno de ellos es el suministro de las vacunas evidentemente

una planificación más detallada y que es posible porque en esa planificación han fallado muchas cosas nosotros por eso hablamos de calendarización prevista

calendarizar de una manera prevista que sabemos que luego tiene que ser dinámica y por eso además añadimos en base a la disponibilidad de las vacunas porque

agentes implicados metodología de trabajo han sido cambiantes y han fallado metodología de salud laboral la distribución específica de las vacunas por osi y colectivos a vacunar porque además la mala planificación

es lo que ha permitido también que en su momento hubiese esos casos de vacunaciones irregulares sobre los que hemos discutido y que en nuestra opinión tampoco han quedado suficientemente clarificados nosotros por estas razones

sí es verdad que más allá del punto uno sí estamos de acuerdo con el resto de la iniciativa no tendríamos tampoco ningún problema en votarla por puntos si el grupo proponente estuviera de acuerdo pero en principio vamos a mantener nuestra iniciativa que va más en la línea de impugnar o pedir al gobierno vasco que planifique mejor

la campaña de vacunación que se garantice el mayor ritmo de vacunación posible porque es verdad que es un elemento científico el ritmo de vacunación es importante

hainbat neurri zehatzak aurkeztu ditugu está claro que todo lo que rodea el proceso de vacunación está sumido en una incertidumbre no solo propio proceso de vacunación y la lentitud del mismo que nos lleva a ser

en vacunar en relación con el resto de comunidades autónomas como ha señalado la proponente de la iniciativa la señora ubera sino que

el tres coma tres por ciento del total de la población vasca inmunizada lo que nos lleva a que no vamos a poder cumplir el objetivo que ya señaló

consejera de salud la señora sagardui de inmunizar al conjunto de la población

creo que esto merece una reflexión esta situación este hecho y pone de manifiesto que nuevamente

como decía no se están haciendo las cosas bien y que adolece del plan necesario para haber afrontado

garantías debidas y también con la transparencia en relación a toda la información del proceso de vacunación colectivos

no solo los grupos siguiendo las recomendaciones de la comisión de salud pública a nivel nacional sino también en virtud de las potestades

de vacunación hay muchas cuestiones inexplicables ayer también tuve oportunidad y este grupo tuvo oportunidad de manifestárselas a la propia consejera no entendemos por ejemplo como se publicó también ayer en varios medios de comunicación lo que ha pasado con las dosis de algunas vacunas que se reciben en una semana

se tenían que haber administrado la mitad si atendemos al criterio de que se reserva la mitad que también podríamos discutir en relación a esta cuestión pero vamos a entender que podría ser lógico que se reservaba la mitad es decir siete mil cuatrocientos pero luego vemos los datos y vemos que

recibidas este dato concreto podríamos de manifiesto otros más pone de manifiesto claramente que las cosas no se están haciendo bien en relación al proceso de vacunación nosotros también coincidimos

receta en estos momentos tanto para nuestra salud como para nuestra economía sin duda es acelerar agilizar el proceso de vacunación y vacunar lo más rápido posible a la mayor población vasca también

y ahí tenemos las cifras de vacunación todo lo que ha rodeado al proceso de vacunación desde el principio

que ha dado la sensación de existir muchas dudas en relación al mismo no ha habido criterios claros

un plan y una planificación del propio proceso de vacunación nosotros lo reivindicamos a través de una iniciativa y también

en relación a la población vasca pendiente de vacunar que lo tengamos claro porque parece ser que los criterios siguen sin estar claros y digo esto también por el propio desconcierto

vasca y en concreto el colectivo de personas mayores personas mayores de ochenta años que no entienden

a personal de una franja de edad entre ochenta y seis y ochenta y nueve años para vacunarse y se están vacunando y que a personas entre una franja de edad de ochenta a ochenta y cinco años todavía

no sabemos los criterios que se están siguiendo en relación al colectivo de personas mayores a ochenta años pero sin duda lo que estamos viendo es que se están produciendo discriminaciones en relación a la priorización que el propio gobierno vasco y el departamento

establecido y fijado en vacunar primero a los mayores de ochenta años ochenta y cinco años y después

tampoco sabemos los criterios que se van a seguir con enfermos crónicos o personas especialmente vulnerables por sufrir patologías

nosotros por fin parece ser que se está también vacunando a un colectivo especialmente vulnerable como son los dependientes grado tres no institucionalizados los dependientes que no están en residencias personas mayores que son dependientes que están en sus casas con un cuidador o personas también con un grado de discapacidad

era una cuestión absolutamente prioritaria y tenemos que decir que claramente ha habido mucha dejación en relación a este

se lo he manifestado a la propia consejera en las comparecencias que se han producido semanalmente como se ha dicho también aquí hay muchos colectivos que en el resto de comunidades autónomas se han vacunado antes que en euskadi eso es un hecho

citar también a los sanitarios en otras comunidades autónomas los sanitarios

del país vasco por lo tanto yo creo que está claro que la sensación que se ha dado con la gestión del proceso de vacunación por parte del gobierno vasco una sensación de cierto caos de desorden de falta de una planificación y ha sumido a la población en una incertidumbre y en una

lógica y que nosotros compartimos por ello ante esta iniciativa que coincidimos con muchos de los puntos que se han recogido

pedimos nuevamente ese plan exhaustivo y riguroso en relación

a los grupos poblacionales que quedan pendientes de vacunar como decía anteriormente estableciendo un orden de prioridad de los mismos

por otra parte nos parece absolutamente necesario también y aquí se ha dado también una cierta sensación de improvisación en relación a que sepamos

que podemos contar creo que no es de recibo que se nos anuncie que se habilitan veinticinco puntos de vacunación

bastante cuantitativo que obviamente obedece a que no hay un plan y una previsión en relación o criterios claros en relación a estas

parece ser que bueno pues hay una intención también de habilitar grandes espacios pero tampoco tenemos grandes noticias en relación a esta cuestión y

los recursos también personales que van a ser necesarios para proceder a la vacunación también de grandes grupos poblacionales que es lo que va a corresponder

alcanzar hasta la edad de sesenta y cinco años nosotros también pedimos al gobierno vasco que el ritmo de vacunación

pero aparte de eso también que se vacune y no se pare la vacunación ni los fines de semana ni los días festivos que vienen ahora

si queremos coger un tren que hace tiempo se nos ha escapado y por otra parte y voy finalizando creemos que también es necesario reforzar el servicio de vigilancia epidemiológica en un momento clave creemos que no se está contando debidamente con los técnicos y con los

algo que no entendemos así se nos ha hecho llegar también sabemos que hay un desconcierto entre los propios profesionales de la sanidad que nos dicen que las decisiones y los criterios que se establecen no fluyen adecuadamente y que hay un desfase entre

o las directrices desde el propio departamento de salud de osakidetza a cómo llegan

facultativos y personal sanitario que tiene que ejecutar estos criterios y finalmente creemos que es oportuno también que se refuerce la formación del personal que interviene en el proceso de vacunación

la línea que mantienen los grupos que apoyan al gobierno creemos que es insuficiente la enmienda presentada no hay ningún tipo de autocrítica ningún tipo de reflexión ni ninguna propuesta

en la estrategia que se ha seguido por parte del gobierno vasco y en relación a las otras dos propuestas pues coincidimos con algunas de las cuestiones que se plantean con otras no

que creo que las diferencias que se han podido manifestar eran salvables y lamento que no se haya hecho un esfuerzo en ese sentido por el grupo de podemos y me remitiré a otras cuestiones en la réplica besterik gabe

gracias señora presidenta los socialistas compartimos la necesidad de acelerar el ritmo de vacunación tanto como sea posible

como la otra porque es cierto que todos tenemos que ajustar los procesos de vacunación para acelerar el proceso de llegar a la inmunización lo antes posible pero también es cierto que esos ajustes deben hacerse sobre los parámetros de seguridad a los que debemos atenernos dentro de un proceso que ha ido evolucionando y que va a seguir

conforme por ejemplo al número de vacunas con las que contemos en el mercado conforme al número de dosis que efectivamente nos acaban llegando de la unión europea y también conforme a las nuevas evidencias científicas que podamos tener sobre esas vacunas

y la agencia europea del medicamento no somos ajenos a la inquietud que el proceso de vacunación está provocando en determinados colectivos y por eso

sino el mayor número de certezas posibles porque lo cierto es que en el proceso de vacunación confluyen circunstancias muy variadas sobrevenidas e incluso

aceptar esto no debe ser excusa para que no exista que existen una estrategia y protocolos claros que traten de abarcar el mayor número de situaciones y evitar cualquier desajuste pero aceptar esto que es una realidad solo nos puede llevar a una conclusión lógica esta estrategia aquí

debe ser una estrategia que se va a seguir adaptando y concretando conforme vayamos contando con más certezas y también conforme vayamos contando con más vacunas miren el pasado tres de marzo en la comisión de salud el departamento hizo pública su intención de inocular todas las dosis que llegaran de astrazeneca al permitir esa vacuna

suponía prescindir de un cuarenta y tres por ciento de la ya conocida y famosa reserva estratégica destinada a garantizar la segunda dosis y supuso un salto cuantitativo que nos permitió acelerar considerablemente el ritmo de vacunación pero como todos saben el ritmo se vio de nuevo afectado por una nueva contingencia la decisión de gran parte de los países de la unión europea de paralizar la inoculación con astrazeneca

se pronunciara sobre la seguridad de esta vacuna en relación a los diversos casos de trombos que habían aparecido y estoy seguro en torno a esta cuestión podríamos aquí tener un debate político en relación a si esta respuesta fue exagerada o no incluso hasta podríamos estar bastante de acuerdo pero lo cierto es que las diferentes comisiones de salud pública de los países optaron por la prudencia

nosotros coincidimos en la necesidad de hacer ahora un esfuerzo para recuperar el ritmo de vacunación que fuimos capaces de alcanzar justo antes del parón

para lanzar un mensaje de confianza y de seguridad en las vacunas y sobre todo

que como ayer apuntó la consejera ha sido definida como segura y eficaz por la agencia europea del medicamento

creo que tenemos una buena oportunidad para conseguir avanzar en el objetivo común de conseguir la inmunización lo antes posible cómo pues si tenemos

la única manera es a través de una estrategia de vacunación que se vaya adaptando precisamente a esa realidad cambiante una estrategia que como no podría ser de otra manera

pero siempre dentro de los parámetros de seguridad y certeza científica

siguiendo las prioridades establecidas por la comisión de salud pública del consejo interterritorial del sistema nacional de salud pero también que se adapte al número de vacunas que vamos recibiendo y que respete los prospectos de las propias vacunas

que hemos presentado porque aquí hoy se han planteado cuestiones muy diversas pero que pueden y deben abordarse conforme a estos parámetros básicamente porque

podemos tener una opinión política pero creo que estaremos todos de acuerdo

hay cuestiones que compartimos y en las que ya se viene trabajando como es asegurar la universalidad y equidad sin crear ninguna discriminación entre pacientes que vivan en zonas urbanas o rurales o tienen dificultades para salir de casa ampliar la coordinación con los ámbitos de prevención laboral

seguir implementando los procesos formativos o el reforzamiento de plantilla que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia pero hay otras cosas que desde nuestro punto de vista merecen

plantear que el gobierno vasco analice con la comunidad científica la posibilidad de priorizar las primeras dosis aunque sea a costa de retrasar la segunda yo les puedo decir que

pero hoy por hoy la recomendación sigue siendo asegurar la segunda dosis y además en el margen de tiempo que las propias farmacéuticas marcan

las comunidades autónomas en el consejo interterritorial por lo tanto el debate científico ya se está dando donde corresponde

no me cabe ninguna duda de que será trasladado a la estrategia de vacunación española y con ello a la de euskadi pero hasta entonces tenemos la obligación la obligación de asegurar las segundas dosis a nuestra ciudadanía para asegurar la inmunización

otra de las cuestiones que se plantean por diversos grupos es el establecimiento de un calendario concreto de cuándo le toca vacunarse a cada grupo de ciudadanos y a mí sinceramente me llama la atención que se llegue a decir que incluso se señala en qué semana les toca

porque es simplemente imposible a día de hoy primero porque el suministro de vacunas está variando semana a semana en toda la unión europea

se van añadiendo nuevos colectivos en las distintas etapas de vacunación como en el resto de los países de la unión europea y precisamente por eso tampoco se establecen referencias temporales porque obviamente dependerán de todos esos factores yo creo que es importante partir de un principio de realidad sobre todo para no generar frustraciones euskadi cuenta con su protocolo como cuentan con él el resto de las comunidades autónomas pero estos protocolos están alineados con la estrategia

y todos ellos están sujetos a sufrir cambios todos los de todas las comunidades autónomas y ninguno de ellos establece cronogramas

y colectivos tampoco los de las comunidades autónomas donde gobiernan algunos grupos que hoy lo piden aquí porque también les afecta que se vayan incorporando nuevas vacunas o no o las es que efectivamente acaban llegando lo que sí podemos hacer

y así recuperar el ritmo de vacunación y por ejemplo establecer el objetivo

hasta el próximo miércoles así como comenzar la semana que viene con la apertura de la campaña de población general de hasta sesenta y cinco años con astrazeneca pero sabiendo eso sí que de momento las cantidades que nos llegan de los laboratorios siguen siendo insuficientes para alcanzar una alta velocidad de vacunación

cumple con la promesa de enviar uno coma dos millónes de profilaxis a la semana a españa durante ese mes

legebiltzarkideok egun on guztioi este debate ya lo tuvimos el dieciocho de febrero y aunque sé que la mesa

me parece oportuno recordarlo más que nada por si alguien me achaca falta de originalidad

mismo argumento no tengo cuerpo para indagar en mis profundidades reflexivas para intentar ser original también es cierto

del que disfrutamos estos días aunque no me confío del todo vistas determinadas tácticas de que esto se mantenga así por mucho tiempo

que la primera dosis de las vacunas ofrece un alto nivel de protección previamente en el mismo párrafo se afirma que la comunidad científica de todo el mundo y las personas responsables de salud pública se encuentran inmersas en estos momentos

a ver o están debatiendo o están evidenciando y como se empeñan en traer debates técnico científicos a un foro preferiblemente de debate político pues vamos a entrar en la ciencia pero eso nos va a llevar a aburrir como ostras a la concurrencia voy a resumir las reflexiones científicas por ejemplo del doctor altmann que tras publicar un artículo en la revista science immunology

dice exactamente cuando el sistema inmune se encuentra por primera vez con una vacuna

primero las células b plasmáticas que se enfocan principalmente a producir anticuerpos estas células tienen vida corta y aunque llenen el cuerpo de anticuerpos durante una semana sin la segunda inyección normalmente entran en declive

cada una de las cuales está diseñada para identificar un patógeno específico y matarlo

hasta que se topan con su objetivo lo que significa que a veces la inmunidad a infecciones puede durar lo importante es que por general no se tendrán muchas células ti

por tanto la dosis de refuerzo es una forma de volver a exponer el cuerpo a los antígenos para iniciar la segunda parte de la respuesta de hecho él continúa eh y ante vacunas ya muy experimentadas y que se han logrado estudiar durante décadas como la

se sabe científicamente que alrededor del cuarenta por ciento de quienes reciben una sola dosis no están protegidos de los tres virus lo que ocurre solo con el cuatro por ciento de quienes reciben las dos dosis termina su cita lo cierto es que en cualquier caso hay gustos para todos los colores pues lo mismo que les he contado en el anterior artículo

que señala que una sola dosis de pfizer otorga el noventa y dos por ciento de esta inmunidad

quien demostraba que con una dosis la eficacia era del cincuenta y cuatro por ciento

se hicieron al muy poco tiempo de empezar a vacunar el treinta y uno de diciembre y el veinte de enero y se hicieron con muestras muy pequeñas no superiores a veinte o treinta personas dicho esto yo mismo puedo concluir que de momento no hay evidencias científicas que estas se dan cuando hay suficientes datos y tiempo experimentado cosa que de momento no se da en las vacunas covid diecinueve

más o menos hace cuatro o cinco meses si el trabajo parlamentario se empeña en solicitar al departamento de salud determinadas estrategias basadas en criterios científicos pues bien convirtamos esta sala en un aula de epidemiología pero hagámoslo en serio con criterios y teorías científicas avaladas por personal científico solvente

de personal experto o supuestamente experto del que solo sabemos el título y el cargo que tiene pero del que no conocemos ni el currículum ni sus publicaciones

y se precipita porque encuentra una vía para incrementar el catálogo de publicaciones de cada cual pero no todas las publicaciones tienen valores iguales y yo personalmente no me creo capaz de diferenciar estos valores científicos solo sé que lo aprobado por las agencias de medicamentos es la doble dosis porque sobre la doble dosis se hicieron los ensayos

por eso ante la duda científica y por tanto ante la falta de evidencia científica lo lógico es seguir vacunando en función de las recomendaciones de quienes a nuestro modo de entender

y la comisión de salud pública del consejo interterritorial que es lo que dice nuestra enmienda podemos discutir aquí de ciencia y cada uno referirse a sus fuentes y a sus currículos pero todo será baldío

porque el foro de quienes saben de esta epidemia concreta y de estas vacunas concretas están donde yo les señalo

mengana en esta televisión hay organismos científicos oficiales que están hechos para esto

está usted señora ubera empeñada en cambiar el criterio del gobierno de reservar la segunda dosis

sabe usted con seguridad que una sola dosis protege con suficiencia lo sabe con certeza científica si es así traiga aquí los datos si no si solo es una especulación de una potencial protección parece mejor ser discreto y no especular en este foro y menos decir que poner menos vacunas que eso es especulativo populista y provoca confusión y aquí estamos para ayudar al menos yo y por otro lado puede usted garantizar que cada semana llega la dosis de vacuna que nos han dicho que van a llegar

es mejor guardar la garantía de la segunda dosis aunque eso suponga un cierto retraso en la vacunación completa aunque realmente no es para tanto en un suponer que lleguen mil vacunas a la semana y que la segunda dosis se ponga a las dos semanas al final de tres

mientras euskadi que guarda la mitad al menos de las pfizer y

tendría quinientos completos y mil con una dosis hombre tampoco es para mesarse los cabellos garantizando además la segunda dosis pues no han sido ni una ni dos ni tres las comunidades que han tenido que retrasar esa segunda dosis por falta de vacunas

por esa falta de vacunas a partir de ahí

lo más concreto posible señalando además un catálogo de medidas que debe considerar para diseñar la estrategia usted sabe porque le han contestado además desde el departamento que existe una estrategia de vacunación con prioridades para las diferentes ocupaciones profesiones y edades que se viene cumpliendo con rigor

pero todo eso en función de las vacunas que van llegando y de las características de cada una de ellas

recibirá cada vasco y cada vasca la vacuna en el peor escenario posible pero bueno sabiendo que unas semanas llega una cantidad la siguiente otra que a veces se para el suministro que cada semana se cambian los protocolos o las poblaciones diana que no se conoce cuándo llegarán las nuevas vacunas contratadas por la ue

y otra infinidad de situaciones usted cree que es posible que cada uno de nosotros sepamos cuándo nos vamos a vacunar

en dos años o nunca porque visto lo que está pasando tampoco voy a descartar que exploten las fábricas un día hay un plan

confíe como confían la mayoría de los ciudadanos en que se vaya cumpliendo la vacunación siguiendo el orden establecido y ya conocido por todos

si un colectivo debería estar antes o después pero discutir no dar la segunda dosis es jugar a científicos quienes ni siquiera

y pretender que se haga un estricto calendario de vacunaciones por la inestabilidad de suministros y la heterogeneidad de características de la vacuna

generará falsas esperanzas y además frustración y ya no estamos para añadir más frustraciones a las que llevamos teniendo

pedirle al gobierno que la vacunación se haga siguiendo las prioridades establecidas en la comisión de salud pública que son insisto los que saben y en función de la disponibilidad de vacunas que son las que se pueden poner mire ya lo dijo rousseau es una previsión muy necesaria

gracias señora presidenta como muy bien ha recordado acertadamente el señor

el pasado dieciocho de febrero vox trajo a esta cámara una moción reclamando al gobierno vasco un protocolo de vacunación claro y preciso ese que cinco

ni los errores más evidentes por ejemplo también están empeñados en sacar rendimiento a una pandemia que enfocan como una oportunidad y no como una pesadilla

también obvian las propuestas de la oposición en este caso incluidas también las de vox

ni siquiera discutieron aquella moción porque lo importante es marcar perfil y no resolver los problemas reales de la ciudadanía su argumento señores es patético solo busca la crispación eso es lo que hoy pretenden ustedes en esta cámara crispar o que de una vez por todas este gobierno asuma su responsabilidad y atienda una reclamación que empieza a ser un clamor en vox lo hemos dicho por activa y por pasiva defendemos un sistema nacional de salud

confirmado los desastrosos resultados de su estado de las autonomías

de medidas restrictivas de desescaladas incluso de campañas de vacunación aunque en este caso es más bien un modelo de campaña de la mayoría y otro más

mejor siguiendo los consejos de expertos que avalan elevados grados de inmunización solo con esa primera dosis si ese ciudadano viviera en euskadi

su particular seña de identidad vacunar cuanto más mejor hacerlo siguiendo un orden claro del que la ciudadanía además disponga de todos los datos

una campaña de información social para luchar contra la creciente desconfianza idénticos criterios aquí y en el resto de nuestro país cualquiera en esta cámara debería de estar de acuerdo con todo esto pero nada más lejos de la realidad

le preguntamos en qué grupo están los trasplantados de pulmón quizá uno de los grupos más

no sabe verdad nosotros tampoco aquí falta mucha responsabilidad y aún más autocrítica las vacunas son la esperanza para millónes de personas y este gobierno está jugando con ellas

hace más de un mes pero ante todo perfil político aunque sea contrario a los intereses de sus votantes y también de los nuestros nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel en esta cámara

y por eso señores parlamentarios debatimos las propuestas traídas a debate por cualquiera de los grupos políticos aquí representados por eso les digo que a nosotros
nos sobra la dignidad que a ustedes les falta muchas gracias eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkariak

bien lo más rápido posible nosotros ahí como decía antes sí estamos

posible pero es verdad que mientras ese debate esté sobre la mesa hasta que ese debate por parte de la comunidad científica no venga de alguna manera resuelto y nos indiquen

que lo mejor desde el punto de vista de la salud pública es inocular la primera dosis

y moderna sin tener en consideración la reserva de la segunda nosotros desde luego hasta que

no sea esa la indicación sí que pensamos que es importante mantener la reserva estratégica de esa segunda dosis en ese tipo de vacunas

qué es lo que no ha pasado y con otro tipo de vacunas como la de astrazeneca hay mayor margen cuando el gobierno cambió su criterio dijo que no había un cambio de estrategia yo no voy a discutir ahora si hubo un cambio de estrategia o no hubo un cambio de criterio yo creo que el señor

lo ha reconocido porque eso permitía una mayor velocidad en la vacunación y en lo que sí espero que estemos al menos de acuerdo todos es que mayor

es bueno pero nosotros sobre todo hoy en nuestra iniciativa y por lo que no hemos

a un acuerdo era en la primera parte pero también con el gobierno en la segunda parte nuestra crítica sobre cómo se está haciendo la campaña de vacunación

los miércoles en la comisión de salud ustedes ya saben yo estoy cansado porque ya

pero sí de cara a futuro porque pensamos que se tiene que hacer mejor de cara a futuro y de momento no vemos

la estrategia se tiene que ir adaptando sí nadie desde luego nuestro grupo no está pidiendo al gobierno que la estrategia sea rígida

hemos dicho en todo momento que tiene que ser dinámica yo he dicho en más de una ocasión que pensamos que tiene que incluir

porque sabemos todos los componentes externos que van a influir en cómo se puede ir desarrollando pero generaría

mucho más concreta que ahora no se tiene esa estrategia de alguna manera es verdad y se ha dicho por diferentes portavoces

estrategia de la unión europea en cuanto a los grupos

tiene unas características diferentes y cada colectivo a los que hay que vacunar en orden de preferencia tiene diferentes características en cada territorio y eso es lo que pensamos que no se ha hecho

ponemos alguno de los elementos donde creemos que se ha fallado y por lo tanto en donde creemos que se debe cambiar y se debe afinar más y se debe corregir para que no se vuelvan a dar los problemas que hemos venido viendo estos meses

lo he dicho antes y está en nuestra iniciativa se dice calendario previsto y en atención además a la disponibilidad de las vacunas

calendario previsto porque además no comprendemos una cosa que se diga lo dice el gobierno vasco pero lo dice también el gobierno de españa del que nosotros somos parte

para una fecha concreta para el verano pero no se puede calendarizar nada cómo se puede prever que vamos a vacunar a equis por ciento de la población para una fecha

que no podemos calendarizar cómo va a ser la vacunación con qué criterios entonces sabemos que se va a vacunar a equis por ciento de la población en determinada fecha se puede establecer un calendario que creemos

pero que ayudaría mucho en la planificación y ayudaría mucho también a despejar esa especie también de carrera por colectivos de por qué no

para saber qué es exactamente lo que pasa por lo tanto nosotros

pensamos que se puede hacer mejor que se puede planificar mejor creemos que se debe planificar mejor pero sí le damos importancia a que mientras los criterios sanitarios no cambien

esté ajustada a planificar esas segundas dosis pero siempre con el objetivo

de acelerar al máximo la vacunación porque el ritmo sí es importante para la cuestión de inmunidad

eskerrik asko presidente andrea bueno nosotros tampoco en ningún momento hemos dicho por aclarar

en euskadi ni mucho menos pero sí hemos pedido desde el principio un plan y es que no conocemos ese plan no conocemos ese plan y cuando

competencias la planificación de un proceso de vacunación

planificar cómo se desarrolla ese proceso corresponde a las comunidades autónomas sí es cierto que se establecen unos criterios a nivel de la comisión nacional de salud pública

de un proceso de vacunación es competencia de la comunidad autónoma de las comunidades autónomas y aquí está claro que el gobierno vasco ha hecho cierta dejación de sus funciones

unas cuantas semanas y a día de hoy lo que pedimos es que se prioricen los grupos pendientes de vacunar con los colectivos que se insertan en cada grupo pero no por capricho sino porque es una necesidad si hubiera dicho plan

y se seguiría un orden y no se vacunaría como he dicho en mi primera intervención a personas de ochenta y dos años ochenta y tres ochenta y cuatro antes que las de ochenta y siete ochenta y ocho y ochenta y nueve

lo que está pasando es porque no hay un plan no hay una planificación no hay criterios claros

las decisiones no fluyen está claro que eso es la prueba manifiesta de que no hay una planificación y un plan yo no voy a entrar en un debate científico podríamos aquí esgrimir argumentos de cómo países

la propia doctora en microbiología de la upv

el propio viceconsejero anunció un cambio en la estrategia de vacunación diciendo que se iban a reservar las menos dosis que es cuando se anunció que se

que fue más bien un acto de propaganda porque luego no se produjo ninguna vacunación masiva fue el gobierno vasco

de que no se podían estar haciendo las cosas como se estaban haciendo que daban los resultados que nos estaban dando y que éramos los últimos en vacunar qué pasa que en otras comunidades autónomas las cosas se están haciendo muy mal y no se garantiza a la población esa segunda dosis hombre no vamos a ser tan frívolos y tan demagogos

el que dijo de poner todas las dosis que llegaban de acelerar el ritmo de vacunación hasta alcanzar la velocidad del crucero si fue el señor illa señor rico

todo el mundo tiene que administrar todas las dosis de vacunas lo más rápido posible tenemos que vacunar vacunar vacunar eso decía el señor

no estamos señalando que expresamente sería cuando le corresponde a una persona vacunar a

lo que no puede ser es que aquí se está vacunando de la forma que se está vacunando hemos conocido porque nos están llegando continuamente noticias de que haya mucha gente que no se le está citando y se está yendo a su centro de salud o porque por

ha conseguido vacunarse llamando ella pero no porque la haya llamado osakidetza está claro que aquí se han reservado muchas más dosis

de manifiesto y el ejemplo de lo que pasó la semana pasada con la vacuna de moderna y ayer no obtuve respuesta ni por parte de la consejera y no se me ha rebatido este argumento cómo es posible si solo se reserva la mitad de las dosis que lleguen catorce mil ochocientos la semana pasada y solo se pusieran

es decir se reservaron mucho más de la mitad por lo tanto yo creo que este dato también pone de manifiesto

no hay una planificación no hay un ritmo adecuado no hay criterios

van a estar desconfiando de cómo se están haciendo las cosas cuando ven que a su vecino de ochenta y siete no le vacunan

que a él que tiene ochenta y siete años no le vacunan y a uno de treinta y dos años le están vacunando es que eso está pasando no son casos aislados estos no son errores

esto obedece a que obviamente las cosas no se han hecho bien y no se están haciendo bien le voy a coger al señor tellería la palabra vale vamos a tener en cuenta

refuercen y cuenten ustedes de una vez por todas ya con los técnicos epidemiólogos y los expertos que tenemos tanto en salud pública como en osakidetza como en esta comunidad autónoma que yo creo

pueden estar a tiempo cojan el tren ya de una vez que hagan caso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

presidenta yo a veces tengo la sensación de que repetimos una y otra vez argumentos cuando

aunque esos argumentos hayan sido rebatidos y hayan sido contestadas las preguntas que se han formulado en torno a todos esos debates pero aquí se viene pues como si no hubieran existido esas sesiones previas como si no hubiéramos debatido de este asunto como si no se hubiera dado

me apena me recuerda la sensación que

primer presidente de la primera república pudo tener al hacer una frase

del diario de sesiones pero es que yo creo que

esa estrategia yo no me voy a pelear

cuando se hablaba de cambio de criterio no cambio de criterio si recuerdan aquí cuando hablamos de la estrategia de vacunación posterior a la navidad etcétera yo le dije a la consejera una

pero yo no me voy a perder en el nombre que no que es que es no querer entender

dosis de vacuna pero que esa estrategia es adaptativa y que va a seguir adaptándose como quieran yo no me voy a perder en el nombre no me van a encontrar en ese debate porque me da igual y yo creo que a la ciudadanía le da igual

no querer entender que la estrategia de vacunación tiene que ser consecuente con una realidad absolutamente cambiante

queremos obviar eso oiga que dentro de un tiempo vamos a contar con una vacuna de una sola dosis lo obviamos y esto lo añado con la calendarización de verdad tan difícil es de entender que cómo se va a poner la semana que le toca a una persona una vacuna si no sabemos

es que yo creo que incidir en eso es querer crear frustración yo no sé si el objetivo es que pongamos un calendario para que luego no se cumpla

por qué esto se dice aquí y no lo hacen por ejemplo el partido popular dónde gobierna denme una comunidad autónoma con un calendario en el que se establezca

le tengo que decir es que no me parece razonable no me parece razonable determinadas aseveraciones cuando usted sabe que la estrategia de vacunación se está desarrollando precisamente a través del grupo de trabajo del comité de expertos del gobierno de españa y las comunidades autónomas de los que cuatro

la misma estrategia que dice que poco a poco se irán metiendo nuevos grupos y colectivos es decir la misma estrategia que dice

un calendario en el que digamos cuándo se va a vacunar a una persona que no está por ejemplo dentro de esos colectivos que todavía los hay y eso lo sabe a mí me llamó mucho la atención y lo traigo a colación por una frase que se ha dicho aquí en la primera intervención decía que

al acuerdo refiriéndose a podemos a elkarrekin podemos izquierda unida que se debería haber hecho

porque si es para mantener la coherencia pues mire yo le voy a decir que elkarrekin podemos hoy ha mantenido la coherencia diciendo que no a ese acuerdo porque tiene una visión muy clara que ha ido diciendo en la propia comisión de salud durante un tiempo

cuando vi esta iniciativa que hoy se habla aquí como se ha hablado por todos los grupos de la reserva estratégica pero ninguno la introdujera en sus enmiendas y yo que suelo revisar la hemeroteca

es cuando se dio el anuncio de varias comunidades autónomas del partido popular que decían que tenían que parar la primera dosis de vacunación

y tenían que priorizar las segundas vacunas por no haber hecho reserva estratégica por no haber hecho reserva estratégica qué casualidad yo me he hecho muy mayor

eskerrik asko mahaiburu andrea el propio documento que se les ha mandado a todos por el departamento de estrategia de vacunación

ya señala los principios sobre los que se va a priorizar la vacuna que es igualdad de dignidad necesidad equidad protección de personas con discapacidad

y es que hay una comisión de expertos en la comisión general de salud pública que tiene expertos en salud pública epidemiólogos expertos en bioética vacunólogos

hay un consejo asesor de vacunas un consejo asesor de enfermedades infecciosas un servicio de epidemiología un servicio de salud pública y usted señora garrido me dice

porque haberlos haylos y son funcionarios no son cargos públicos

menos los epidemiólogos han catalogado

y por cierto si no se habían fijado en la página ciento treinta y uno de ese documento en el apartado de recomendaciones a parte de otras señala taxativamente se mantendrá la pauta de dos dosis en las poblaciones que se están vacunando

luego en febrero que hay una actualización del documento que se va actualizando lógicamente añaden la de astrazeneca para que se entre diez y doce semanas

vacunar lo antes posible sí nosotros también somos partidarios todo el mundo es partidario pero no trasladen la carga de la prueba a quien tiene que vacunar

o a quien ha contratado las vacunas no a quien tiene que vacunar que pone con los criterios establecidos por epidemiólogos expertos las vacunas

el problema es que tengo la sensación de que les manda pero en cuanto ven que son un poco potolos pues que la página tres paran y este claro tiene ciento ochenta páginas y hay que leerlo todo porque ahí aparece

ahí aparece que las personas con más de sesenta años son prioritarias ahí aparece

que hay que mantener alerta la farmacovigilancia ya realmente

no me meto en eso porque ojalá nos llegaran

estoy seguro que el departamento de salud contaría con todo el mundo para poder ponerlas cuanto antes incluso las mutuas que claro también ha habido grupos que han criticado que

hayan puesto las vacunas las mutuas porque en el fondo en el fondo en términos generales no han cambiado el modelo de debate pedir que se abra la mano

pedir que se cierre y luego criticar que se prohíba cualquier actividad

en la recámara para disparar al gobierno juegan conscientemente a confundir

la confunden permanentemente porque miren

que no sé cuántos años tiene voy a decir ochenta y seis para que si me oye

porque astrazeneca todos saben que llegan más dosis se ponen más rápido no se espera a guardar nada porque hay que ponerla en doce semanas lo cual tiene toda su lógica

y se van poniendo como se va poniendo y por tanto mi hijo que es prioritario según el criterio que ha establecido para mí no es nada prioritario yo soy más prioritario que él pero

porque se dedica una profesión que es prioritaria pum treinta y uno años y vacunado

y eso no es criticable pero lo hacen lo utilizan ya no sé a qué apelar no se les ha ocurrido colaborar con el gobierno criticar un poco porque usted señora ubera pide al gobierno valentía pero

y el gobierno es valiente pero no es osado ustedes deberían ser valientes para intentar colaborar más con el gobierno eso sería valentía y nos gustaría por cierto que tuvieran una planificación real de lo que van a hacer porque yo recuerdo creo que fue octubre o noviembre la portavoz de su grupo hizo una rueda de prensa mostrando todo su apoyo en la pandemia al lehendakari y cuando terminó la rueda de prensa ella lo recordará yo me acerqué a agradecérselo

de una conversación privada en doce horas ya estaban desde gipuzkoa criticando todo lo que estaba haciendo el gobierno vasco aclárense ustedes planifiquen lo que quieren hacer y sean valientes eso sí aún y todo al gobierno y especialmente al departamento de salud les seguiré y nuestro grupo le seguirá trasladando sus ánimos para que a pesar de oír lo que oyen continúen por donde van que lo están haciendo muy bien porque nosotros
y una mayoría de la sociedad creemos en ellos muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

pobreza somos conscientes de que la pobreza energética la pobreza infantil son expresiones

de una gran parte de la sociedad en euskadi

que todavía no logra proteger a todas las personas y además este fenómeno y en este caso de la pobreza energética tiene derivadas también en materia obviamente de vivienda y de protección a las personas consumidoras pero además de esto pensamos que hay bienes y hay servicios básicos para los cuales es indispensable defender su carácter social las condiciones materiales indispensables para la vida se deben de proteger

intergeneracional de la pobreza nos gustaría cambiar el modelo obviamente baina ekimen

eragiten zion así mismo por ejemplo intermón oxfam también alerta en su informe de que casi ochocientos mil personas en el estado español

el impacto de la pandemia y de la crisis económica

las personas más jóvenes las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y las personas migrantes son los colectivos junto a otros pero son los más

en este punto y solo hay que ver estos datos que acabamos de comentar y hacer un pequeño contraste en materia energética esos datos frente a la cuenta de resultados de iberdrola en el año dos mil veinte tres mil seiscientos once millónes de beneficio más del cuatro por ciento que en el año dos mil diecinueve un tercio del presupuesto vasco solo en beneficio de una sola empresa que se dedica a la energía

a los macrobeneficios de determinadas empresas

que tuvo que atender durante el año dos mil diecinueve en euskadi para hacer frente a la pobreza energética en concreto

tenía que elegir a la hora de pagar gastos básicos no estamos hablando de otro tipo de gastos sino de elegir entre una alimentación adecuada

su vivienda porque no es solo pobreza energética no poder pagar las facturas sino también es tener que renunciar a otro tipo de gastos sobre todo además si son básicos para poder pagar estas egia da egoera hauek arintzeko

porque sabemos las miles de personas que se quedan fuera de la renta de garantía de ingresos también sabemos porque este parlamento ha trabajado mucho en ese sentido y hay muchas denuncias de colectivos sociales también en torno a ello

que necesitan acceder a ese tipo de prestaciones sociales

a estas ayudas a estas prestaciones mejor dicho tenemos que añadir otras como el bono social eléctrico

un problema que es un sistema que no termina de llegar a todo el mundo que lo necesita porque se desconoce

además tenemos una ventaja en los últimos meses

y para lo que afecta a las personas también consumidoras vulnerables es que se ha reforzado la figura de la persona consumidora vulnerable y las personas potencialmente beneficiarias

de los primeros meses de la pandemia y también

mediante el real decreto de diecinueve de enero del consejo de ministros de protección a las personas vulnerables impulsadas por el ministerio de consumo se ha ampliado la figura del consumidor vulnerable antes solo se refería a las personas que tenían dificultades

con lo que decía antes de las prácticas comerciales de las eléctricas que manipulan o intentan disfrazar

ahora con esta figura del consumidor vulnerable que hay que trabajarlo también en las comunidades autónomas también estarán

las personas por motivos sociales culturales generacionales y también geográficos algunos ejemplos de los nuevos perfiles que protege esa nueva figura de la persona consumidora vulnerable personas mayores con un nivel bajo de digitalización que esto tiene mucho que ver con lo que decía al principio de que

al bono social y tampoco a algunas ayudas adolescentes con dificultades para acceder a recursos tecnológicos personas

tendenciosos por ejemplo a nivel geográfico habitantes de pueblos sin acceso a todos los servicios o a elegir los

en las ayudas de emergencia social como en otras prestaciones como lo que decía también en el bono social la pandemia no ha ayudado a la gestión de las mismas ha habido demoras derivadas

plazos para obtener determinados certificados o justificantes

afectan a personas que tienen en el caso de las ayudas de emergencia social

inmediata y no puede ser que por burocracia esto se retrase hori dela eta adibidez bi mila hogeian krisi urte batean

gorriaren aburuz también este fenómeno el de la pobreza energética

desde el punto de vista transformador se tiene que abordar de forma decidida por los gobiernos en este caso por el gobierno vasco en coherencia con su propio compromiso

al derecho al acceso a una energía asequible y no contaminante por tanto es obligado en este caso para el gobierno vasco perseguir ese fin

bai tres cosas muy concretas que hemos transaccionado y que proponíamos también en nuestra proposición

la primera flexibilización de los criterios de acceso a las ayudas de emergencia social compromiso de aumentar las cuantías y crédito suficiente para que nadie se quede ningún solicitante se quede sin acceso a estas líneas de

la segunda campaña de sensibilización a la ciudadanía sobre las posibilidades de acceso al bono social como nuevo consumidor vulnerable por el covid o por la nueva figura

en general y el tercero obviamente no renunciamos a nuestra propuesta de cambiar

seguiremos insistiendo y por eso introducimos el mandato

al gobierno del estado y también al gobierno vasco en sus competencias para garantizar la producción distribución y comercialización de electricidad como bien

las medidas que sean necesarias para garantizar los suministros vitales básicos para los hogares con bajos ingresos económicos estamos hablando de un bien de mercado que debería ser un derecho básico de la ciudadanía el derecho al bienestar energético

gracias presidenta señorías bien quería retomar la primera frase que ha hecho el señor zatón

que usted habla de que la crisis del dos mil ocho ya dejó entrever las necesidades bueno pues yo conozco una persona muy cercana

las necesidades de las familias vascas nosotros

nos deberíamos de preocupar mientras que una persona tenga necesidades ustedes han dado datos del número de personas que se encuentran

para mí esto es muy importante y entonces sigo

por la covid la causante del problema de la pobreza energética o la imposibilidad de acceder a recursos para una vida digna este es un problema

agravado a día de hoy no lo niego ahora los servicios sociales de base han visto agravado su nivel de actividad que ya era

de las ayudas de emergencia relacionándolas con la pobreza energética y voy a realizar de las mismas porque sé que aunque para miles de familias son necesarias no nos conformamos con eso de menos da una piedra creo que tenemos que buscar la excelencia creo que tenemos que buscar la sensibilidad suficiente para reorganizar el sistema de ayudas en euskadi para que lleguen a todas las personas que lo necesiten de una manera justa y nos sentimos satisfechos con nuestro sistema de ayudas

sino que esa autocrítica nos va a hacer pensar cuáles son las necesidades reales mejorar en cuáles son las necesidades reales mejorar

a las ayudas y mejorar en las formas en los documentos en los requisitos

han de llegar a todos y lo vuelvo a repetir porque es importante a todos los que lo necesiten la sociedad tiene que sentir que los criterios justos y adaptados a la casuística de los ciudadanos

repito hace tiempo venimos planteando la reestructuración del sistema de ayudas de euskadi es innegable que las familias están haciendo uso de ellas pero

algo hay que no se está haciendo bien y debemos mejorarlo mire voy a empezar por esta crítica

los criterios de acceso llegan a los ayuntamientos

por lo tanto desde el mes de enero los ayuntamientos paralizan solicitudes de ayudas de emergencia que saben que seguramente podrán conceder a partir del mes de marzo pero mantienen a la espera a muchas familias que tienen esa necesidad

tres meses esperando a que la administración haga su juego bien lo dice la palabra ayudas de emergencia la emergencia es

ni un mes ni dos por eso las ayudas de emergencia son para reparar unas gafas de vista son para el pago de las facturas energéticas son para el pago de la reparación de un microondas que necesitan para calentar su comida

casos no solo pobreza energética por eso le doy mucho valor a este sistema de ayudas que

en euskadi y esta reflexión globalizada es tan necesaria que no he podido solo hablar de lo que es la pobreza energética porque cuando uno sufre pobreza energética

pobrezas no solo podemos hablar de pobreza energética y nosotros cuando planteábamos

de podemos lo que decíamos es que cuando las personas van acuden a los servicios sociales de base a solicitar una ayuda de emergencia o simplemente una ayuda ni siquiera saben lo que es una ayuda de emergencia primero han pasado por una reflexión vital de la necesidad que tenían como norma general llegan con unos problemas muy agravados y muy cronificados es decir uno no tiene un problema económico y acude directamente a los servicios sociales de base por lo tanto

indispensable que se haga con velocidad la tramitación

y en nuestra enmienda en el primer punto pedíamos que para hacer frente

se pudiera compartir o verificar entre diferentes administraciones de manera automatizada la información necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos solicitados para acceder a esas ayudas tan necesarias y en el segundo punto

más necesitan las ayudas de emergencia es que se garantice una dotación suficiente para estas ayudas porque no podemos llegar a la excusa de decir no hay suficientes recursos se acabó se cierra el grifo

la emergencia acompañada por lo tanto no podemos trabajar con un presupuesto finito sino que lo que tenemos que hacer es hacer una reflexión generalizada de todas las ayudas entre ellas las ayudas de emergencia social

geratu da el importe máximo de las cuantías destinadas

desde dos mil diecisiete en novecientos euros pese a que por ejemplo la encuesta de necesidades sociales del propio gobierno vasco recoge que la proporción de personas que sufren el frío en invierno sin conseguir disfrutar de una temperatura adecuada muestra un cambio de tendencia negativo en dos mil dieciocho

y unas ayudas en cuya tramitación parece que se están generando problemas fenomenoa eta milaka herritarren bizipena

hori ere ez y decía el señor tellería antes que se trata de ser valiente y no osado

miren cuando preparábamos este tema mi compañero ander rodriguez me comentaba que tiene un amigo aficionado a la etiología

roja una hipótesis evolutiva que propone que los organismos deben cambiar constantemente para sobrevivir para mantenerse

deben cambiar deben adaptarse para mantener su capacidad de protección y es lo que no está pasando aquí y añado a esto otra reflexión en mi intervención he mencionado varias veces la encuesta de pobreza y desigualdades que elabora el gobierno vasco y se menciona mucho también en esta cámara y la he mencionado porque el objetivo principal de esta encuesta es o debería ser

es decir se trata de que la realidad que nos muestran esas encuestas

quizá deberían ustedes hacer una reflexión sobre las situaciones en las que un gobierno produce encuestas pero cuyos resultados no afectan

no sé piénsenlo y nos decían cuando presentábamos nosotros la ley de bienestar energético que nuestra propuesta no era

familias en situación de vulnerabilidad energética y más aún en esta situación de pandemia pero no solo nos preocupamos sino que desde las distintas instituciones y desde el compromiso

nos ocupamos porque uno pudiera inferir de su iniciativa

sencillamente sería faltar a la verdad y más en lo que se refiere al papel de los socialistas al respecto de la cuestión haciendo un simple repaso

que esta cuestión en concreto se comenzó a tratar en esta cámara allá por dos mil trece y fuimos precisamente los socialistas en boca de la entonces parlamentaria natalia rojo

desde la oposición quienes propusimos ya en el año dos mil quince una enmienda para la creación de un fondo específico no vinculado a las ayudas de emergencia social para atender a familias en situación de vulnerabilidad social a partir del año dos mil dieciséis se consolida en el presupuesto como una partida permanente y no solo eso sino que además se

las ayudas de emergencia social o el bono social sin ir más lejos y en el caso concreto de las ayudas de emergencia social que en buena medida son el soporte económico que garantiza que muchas familias vascas

al pago de gastos ordinarios y evitar situaciones de exclusión social y también de pobreza

del año dos mil veinte veintisiete millónes y medio que a la vista de la situación derivada de la pandemia y sus consecuencias se amplió en dieciséis millónes

llegando a un total de cuarenta y tres millónes y medio de euros presupuestos partidas que prácticamente se han mantenido en lo que se refiere

estas acciones se suman a los esfuerzos que en esta materia están realizando ayuntamientos y diputaciones en concreto en gipuzkoa bajo el liderazgo socialista el departamento de medio ambiente con josé ignacio asensio a la cabeza se creó el observatorio de pobreza energética herramienta que

no solo nos da una radiografía en el territorio sobre esta cuestión ayuda a la planificación y orientación de las políticas y acciones para la reducción de la pobreza energética de una manera estructural

del gobierno de coalición partido socialista de euskadi y partido nacionalista vasco se renovó el compromiso con la lucha contra la pobreza energética refrendando

primera refuerzo de las actuaciones de prevención y abordaje de las personas sin hogar de la pobreza energética y de otras situaciones de pobreza que afectan a personas especialmente vulnerables mayores jóvenes

atención a quienes afrontan situaciones de discriminación múltiple y o carecen de red de apoyo social como por ejemplo las personas en situación de soledad no deseada en segundo lugar el impulso de un programa de garantía infantil como elemento clave de una estrategia global contra la pobreza infantil en línea con las recomendaciones de la unión europea mejorando la renta de garantía de ingresos

a cargo que incluye también por supuesto casos de pobreza energética en tercer lugar la puesta en marcha de un observatorio de la discriminación en cuarto lugar desde el departamento de vivienda dirigido por el socialista iñaki arriola el impulso

de parque público de viviendas con criterios de eficiencia energética y digitalización incluyendo también la estrategia para combatir la pobreza energética todo ello mediante la

atención también a los aspectos relacionados con la eficiencia energética condiciones para garantizar la salud el confort o eliminar el riesgo de pobreza energética a lo que debemos de añadir el impulso a las políticas de alquiler social de viviendas o políticas en relación

habitacionales para personas en riesgo de exclusión de exclusión

la protección social de las personas más desfavorecidas y evitar situaciones de pobreza energética todos ellos compromisos para hacer de euskadi un territorio

con garantías de acceso universal a servicios energéticos asequibles fiables y modernos a nivel nacional el compromiso socialista tampoco se queda atrás en dos mil dieciséis el partido socialista obrero español propone una iniciativa en el congreso cuyo objetivo fundamental era

el suministro de la energía un derecho social básico y que los consumidores vulnerables pudieran acceder a una tarifa social en función de sus ingresos

que se encuentren en situación de pobreza energética financiando

y el consumo real a través de los presupuestos generales del estado ciertamente conseguimos un acuerdo que fructificó en un real decreto ley que establecía que el bono social lo sufragaran las comercializadoras y que no se permitían los cortes de suministros a los consumidores en situación de pobreza severa a día de hoy los socialistas desde el gobierno de españa

para la transición energética y la protección de los consumidores este real decreto ley será lo que soporte la

energética dos mil diecinueve dos mil veinticuatro estrategia que ha sido elaborada por el ministerio para la transición ecológica estrategia que ha sido sometida a consulta pública con un documento final que incorpora las aportaciones de la sociedad civil

la estrategia establece por primera vez una definición de la situación de pobreza energética y del consumidor vulnerable realiza un diagnóstico de la situación en españa

objetivos de reducción de este problema social que afecta a más de tres millónes y medio de personas en nuestro país la estrategia plantea cuatro ejes de actuación con diecinueve actuaciones concretas entre ellas la creación de un nuevo bono social energético universal para todos los suministros y de concesión

y se amplía en cuatro meses el periodo previo a que la empresa suministradora corte el servicio por impago se impulsa además la rehabilitación exprés a través de planes renove de electrodomésticos más eficientes

de edificios más eficientes energéticamente en definitiva nosotros no podemos aprobar su iniciativa o bien porque las acciones que ustedes

ya se están realizando a través de otros instrumentos y en otros casos porque no compartimos la orientación que ustedes proponen en cualquier caso a mí no me cabe ninguna duda que este es un tema esta es una cuestión que desde luego ocupa también buena parte de la acción de este gobierno al igual que la de otros gobiernos en los que participamos los socialistas desde esa preocupación nosotros ponemos instrumentos ponemos políticas al servicio de esas personas que están sufriendo esta lacra que esperemos y deseemos

que no sea una de las cuestiones que precisamente deban preocupar a este gobierno en la medida en una proporción en la que esta problemática

horregatik esaten duzuenean el parlamento vasco insta al gobierno vasco y al resto de las administraciones competentes a aprobar de manera inmediata las solicitudes de ayudas para hacer frente a la pobreza energética

cuando dicen el parlamento vasco insta al gobierno vasco a coordinarse con el resto de administraciones públicas vascas para planificar y garantizar la dotación de fondos suficientes para las ayudas de emergencia social vinculados a la línea específica para hacer frente a los gastos de energía

que en el actual presupuesto también hay un aumento sustancial en esta materia en relación con el presupuesto del año anterior creo que se manifiesta bien a las claras la voluntad de este gobierno de atender las necesidades que se requieren

que vienen a suponer en los números actuales en torno a una octava parte del conjunto de las aes en tercer lugar

incluyendo la actualización en torno a la aprobación de la nueva categoría de consumidor vulnerable con derecho a la percepción del bono social del real decreto ley treinta barra dos mil veinte hombre esto es una normativa estatal aprobada por el departamento de ustedes del señor garzón hagan ustedes la campaña

vamos a dejar aparte el debate sobre la invasión de competencias o no y luego vienen aquí a hacer que nosotros paguemos una campaña de sensibilización en torno a la normativa que ustedes han aprobado madrid háganlo conoce usted alguna campaña al respecto

ustedes son parte por un lado a elaborar y aplicar medidas urgentes para frenar la especulación

su producción distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía pues adelante señor martínez háganlo donde corresponda

en el gobierno español que es donde están ustedes yo creo que

contarán al menos con nuestro apoyo para terminar

sociales del conjunto del estado español ante un gobierno que para dos mil veintiuno prevé un incremento en quince millónes de la partida destinada a ayudas de emergencia social hasta un total de cuarenta y dos coma cinco millónes

ante un gobierno que prohíbe la continuidad de los programas incluidos en el fondo inor atzean utzi gabe con una partida ocho coma seis millónes de euros más uno coma tres millónes del programa aukerak suspertzen

en cuanto a suministro vital más básico del programa azken sarea indartzen que da cobertura a las necesidades básicas para personas que no pueden solicitar las aes

alternativas de alojamiento con apoyo social para personas sin hogar acogidas en refugio durante el confinamiento ante un gobierno que si fuera necesario ha manifestado estar dispuesto a reactivar los programas guztion artean reparto de productos de primera necesidad y apoyo social

un programa y una dirección clara

pero no la hemos visto apropiada para euskadi y por eso

no hemos podido llegar a un acuerdo en definitiva por momentos leyendo la iniciativa bueno pues más de una vez hemos tenido la impresión de que

otra serie de realidades propias

interpusimos la correspondiente enmienda y bueno ha sido

gobernua sostengatzen duten alderdien bozeramaileekin ba bueno reconocen reconocen que hay problemas pero no hay cambios si leen la iniciativa y si repasan lo que yo he dicho en toda mi intervención no lo que todos traemos previamente preparado

aquí no hay nada o todo no funciona sino hemos dicho hay una serie de instrumentos que los pretendemos mejorar

esperemos pero esperemos y además ya saben que desde nuestro grupo si es para expandir derechos

pueda acceder aunque lo ideal sería que nuestro sistema económico produjera y repartiera la riqueza para que nadie tuviera que acceder a esas prestaciones

pero la iniciativa usted decía señor andueza coincidimos en la preocupación sí

ahondar en lo que se está haciendo y mejorar en lo que se está haciendo y decía el señor urrutia coordinación bueno pues hay que mejorar esa coordinación sino

y escuchen las solicitudes y las quejas que hacen desde esos ayuntamientos

a lo que estábamos hablando prácticamente en cuestión y luego

muchas iniciativas en este parlamento no solo en la legislatura en la que nuestro espacio político no estuvo representado en este parlamento pero que también a través de nuestras iniciativas ayuntamientos y diputaciones llevamos a las instituciones y de

mejorarlo y no señor urrutia no ha sido una iniciativa representada en otros parlamentos autonómicos

escrito de casa y no ha hecho el esfuerzo de contrastarlo yo creo que

iba a decir de otra manera pero lo voy a decir así prácticamente todo lo que presentemos

documentos con coincidencias pero luego llegamos aquí y

pero una proposición no de ley que está buscando mejorar lo que hay

competencias de consumo unión europea gobierno de los estados y en nuestro caso comunidades autónomas repásese también las competencias que tiene el gobierno vasco en materia de consumo

lo que aprobó el real decreto de consumidores vulnerables se ha hecho además y se está realizando una campaña permanente de información pero es una lástima que no esté aquí el señor hurtado pero el señor hurtado estuvo con el señor garzón reunido preparando precisamente estas cosas es lo que me sorprende

cuando es una materia que entre el gobierno de españa el gobierno vasco se está trabajando porque es una competencia compartida que viene de la unión europea pasa por los estados

y se gestiona desde las regiones naciones comunidades autónomas como cada uno se siente

y es que cuando hablamos de que hace falta una campaña de sensibilización es que si vamos al portal de kontsumobide aquí los datos no hay ninguna sola referencia a la nueva figura de consumidor vulnerable que está aprobada en enero

ni un acuerdo en eso por qué no ha podido ser posible un acuerdo en esa materia

sobre el bono social eléctrico es de cuando se aprobó en dos mil diecisiete no de ninguna de las actualizaciones que ha habido durante el año dos mil veinte ni la nueva figura del consumidor vulnerable digo bueno

en realizar una campaña de información para que la ciudadanía pueda acceder a lo que por ley y por derecho le corresponde nos podemos poner de acuerdo tengo que pensar

que es absolutamente innegable y ese ha sido mi deseo en que si alguien ha puesto encima de la mesa y ha traído a este parlamento el debate

y si hay medidas concretas que se han puesto en marcha para paliar este problema que yo evidentemente no voy a ser quien diga que no existe he reconocido que evidentemente por desgracia existe hemos sido los socialistas por eso me he empeñado en desgranar todas y cada una de las medidas y de las políticas que se han puesto en marcha en este país en euskadi y en españa y que han venido de la mano de los socialistas para intentar paliar este problema otra cosa es que eso no se quiera reconocer

que en mi intervención he querido resaltar decía el señor martínez reconocen que hay un problema y no hay cambios sí

y desde el dos mil trece que fue la primera vez en la que en esta cámara se debatió sobre esta cuestión hasta ahora le he relatado absolutamente todos los cambios que ha habido

especialmente desde la llegada del gobierno socialista al gobierno de españa

y ahora cuál es nuestro papel desde el gobierno de euskadi desde los dos grupos que sustentamos a este gobierno efectivamente hay un papel muy importante de los ayuntamientos y de las diputaciones ayuntamientos en los que muchos de ellos en los que principalmente

al mayor porcentaje de población en la que estamos los socialistas muchos de ellos liderados por nosotros y las diputaciones en las que también participamos ya le he dicho cuáles han sido

en marcha la diputación de gipuzkoa en un departamento liderado repito por los socialistas y claro que el papel de los ayuntamientos es importante porque en muchos casos y no de ahora

son los que complementan las ayudas de emergencia social cuando las partidas que destina el gobierno vasco no llegan son los ayuntamientos que también hay que poner en valor el papel

y desde luego en facilitar a esos ciudadanos y ciudadanas que tienen para que conozcan que tienen una serie de prestaciones una serie de ayudas

a la tramitación claro que tienen un papel importantísimo no seremos nosotros quienes lo neguemos entre otras cosas porque hemos participado

y porque estamos haciendo posible que eso se siga realizando en fin yo como decía ahondar en lo que se está haciendo es precisamente

no quiero reiterarme en lo que ha dicho el señor urrutia pero desde luego nosotros en lo que se refiere a nuestras competencias como partido en todos los gobiernos estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y efectivamente el señor hurtado estuvo con el señor

tiene una campaña específica relativa a la cuestión de la pobreza energética cosa que

señor garzón en su campaña habla de consumidores vulnerables pero no

que están en riesgo o que están padeciendo una situación de pobreza energética lo que desde luego nunca voy a dejar de hacer es poner en valor lo que hacemos los socialistas en todos los gobiernos en los que estamos participando y desde luego que esta situación

que están viviendo muchas personas pero desde luego a ningún gobierno y mucho menos en aquellos en los que estamos participando los socialistas se le puede negar el compromiso los avances y desde luego el trabajo

usted decía afrontar toda esta cuestión con la idea de menos da una piedra y yo creo que nosotros nunca hemos abordado

los temas relativos a pobreza etcétera con la mentalidad

recientemente mi compañera la señora arrizabalaga publicaba en la prensa un artículo en el que hacía comparativa de cantidades con países de esos que solemos decir que nos queremos parecer y ciertamente por ejemplo en la materia de cantidades quedábamos bastante bastante más

de reformar el sistema de la necesidad de una reflexión genérica sí y yo creo que bueno espero que no tarde en llegar la reforma de la ley de garantía de ingresos de la renta de garantía de ingresos y creo que en ese marco podremos

realizar las reflexiones y las reformas oportunas y decía si nos sentimos satisfechos hombre

ni problemas ni aspectos que haya que reformar kortajarena andrea

honako hau esaten zuen cuando hemos hablado de pobreza y desigualdad en gipuzkoa y que gipuzkoa es uno de los territorios

pero también es verdad que la diputación foral de gipuzkoa gipuzkoari buruz hitz egiten dut tiene como uno de sus objetivos reducir la desigualdad ser un territorio con menores tasas de desigualdad

euskadiri buruz doa y yo sí creo que avanzar en la

es difícil cuando tienes tasas de desigualdad relativamente bajas y eso yo creo que hay que reconocerlo iruditzen zait ez dela

de beneficio y parte de mi intervención

a decirle que ustedes tienen buena ocasión de hacer en el gobierno en madrid lo que piden hacer aquí

por decir uno por mencionar uno que micrófono micrófono en ristre decía solo si gobierna unidas podemos vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer solo van a bajar

se lo repito una vez más adelante yo no creo que encuentre en el partido nacionalista vasco ningún tipo de obstáculo

si van por esa vía y si consiguen bajar la factura de la luz y

yo me leo lo que los grupos presentan y escucho lo que los distintos portavoces dicen y lo traigo preparado de casa básicamente porque me gusta preparar los temas

usted ha hablado del aspecto del consumidor vulnerable

bueno podrían escuchar ustedes las quejas que existen sobre

y en la gestión de esas figuras del bono y demás que salieron a partir del real decreto treinta barra dos mil veinte porque la verdad es que realmente a lo que respecta a las comunidades autónomas y si

es correcta con respecto a la nuestra pues bueno ustedes lo que hacen es básicamente usar de la estructura de trabajo de las autonomías por no tener una
propia amaitu mesedez sobre las competencias

azkena y del afán recentralizador

señora presidenta señorías proponemos hoy a esta cámara la implantación de una figura

de la comunidad autónoma vasca a partir de ahora si les parece utilizaré el término enfermera en vez de enfermero

muchísimas mujeres que ejercen esta labor tan importante

es posible que algunos de ustedes consideren que esta figura no es estrictamente necesaria pero la existencia de una enfermera en cada centro escolar no es un lujo es una necesidad y mucho más en las circunstancias actuales no solo porque ahorrará sufrimiento y costes económicos sanitarios

y repercutirá positivamente en la calidad de vida de toda la comunidad educativa los centros educativos son el lugar

y las familias necesitan que en ellos esté adecuadamente garantizada la asistencia sanitaria la enfermera escolar la podemos definir como el profesional sanitario

que dentro del ámbito del centro educativo y de acuerdo con el proyecto educativo del mismo se encarga de proporcionar la educación sanitaria la asistencia

de toda la comunidad educativa con el objeto de optimizar la salud

la actual pandemia del covid ha puesto de manifiesto su necesidad urgente su necesidad imperiosa en este mismo momento pero su conveniencia era ya evidente desde hace tiempo y sin duda

las circunstancias de la actual pandemia de hecho este tema tiene una larga historia bastante larga se empezó a hablar de esto hace aproximadamente dos siglos cuando el doctor malcolm moris planteó la necesidad de una figura de este tipo en el congreso de higiene y demografía celebrado

lamento que todavía hoy estemos aquí discutiendo si esto es necesario o no llevamos en ese sentido

inglaterra y estados unidos la enfermera escolar está presente de forma habitual en los centros educativos en estos países la figura de este profesional de la salud supone un referente dentro de la escuela accesible para todos los miembros que constituyen el ámbito educativo la enfermera escolar en estos países

educativa preventiva clínica y asistencial fue

cuando se establecieron en inglaterra las principales funciones de esta profesión durante la primera reunión de la sociedad de enfermeras escolares que incluían la atención de dolencias e higiene la supervisión de los hogares y el entorno familiar la prevención frente al contagio de enfermedades infecciosas y no infecciosas la detección precoz

en el año mil novecientos dos apareció en nueva york la primera enfermera escolar conocida de la historia en mil novecientos dos

a las que hoy desde aquí podemos rendir un cierto homenaje atendieron con unos recursos muy escasos

durante treinta días en realidad era una obra social pero también era un experimento

y fomentó entre las familias de estos niños pautas correctas

así como la prevención de enfermedades pasado un mes

demostraron que los beneficios eran claramente evidentes

y por este motivo la figura de la enfermera escolar se fue instaurando dentro de los centros educativos de nueva york hasta alcanzar la cifra de cuatrocientos enfermeras escolares

en europa los primeros datos sobre la enfermera escolar surgen en inglaterra

que supuso la consolidación de la enfermera escolar también en países como en escocia o en suecia en españa la figura de la enfermera escolar como se conoce hoy en día surge hace aproximadamente treinta años en los centros públicos de educación especial de madrid la institución pionera en españa en la implantación de este profesional sanitario es el actual colegio público de educación especial maría de soriano y desde entonces hay una larga historia de avances legislativos en las diferentes comunidades autónomas hoy en día

esta figura profesional se encuentra respaldada por la ley orgánica de educación

un ejemplo es madrid donde actualmente hay alrededor de seiscientos enfermeras escolares la comunidad de madrid es donde más implementada está la figura de este profesional sanitario pero no es la única en comunidades como castilla la mancha

cuentan con enfermeras dentro de algunos colegios y en otras como murcia o valencia también se está realizando una implantación progresiva de estos profesionales sanitarios hay que destacar que la enfermera escolar es un tema que ha sido debatido en casi todos los parlamentos autonómicos actualmente solo se encuentra legislada en madrid y valencia y es muy curioso por cierto ver

porque lo que muestra claramente es que es una figura que produce cierta

hay gente que no lo tiene claro pero esto parece a mí me parece que es un camino

pero para aclarar esto porque siempre está el problema de es estrictamente necesario

las posibles funciones de una figura de este tipo en un centro escolar

un pequeño listado uno puede colaborar en el diseño e implementación de los aspectos sociosanitarios del proyecto educativo del centro

se obvia dos puede formular propuestas para la inclusión de contenidos docentes adecuados a cada nivel puede atender problemas de salud de emergencias pérdidas de conocimiento una herida un dolor de cabeza molestias de estómago un traumatismo leve

de ser atendidas por el centro de salud requieren retrasos trasladados etcétera y son cosas leves que se pueden atender al momento de la misma forma que pasa en cualquier centro laboral

los alumnos o que tienen los profesores cinco prevención de embarazos no deseados enfermedades de transmisión sexual seis atención a los alumnos que puedan presentar síntomas de bullying o de abusos o violencia tanto en el centro escolar como en sus hogares y formación de los profesores para que estén atentos a estos síntomas

uso adecuado de la medicación en fin es un listado prácticamente infinito de posibles

de adaptación que puedan necesitar algunos niños por sus especiales circunstancias sociales o sanitarias coordinación y colaboración del centro educativo con los centros de salud de su comunidad

asesoramiento sobre la seguridad de prácticas de educación física o de laboratorio

seguimiento de los alumnos que por razones de salud están hospitalizados o en casa en fin

más allá de estas labores habituales la normativa de la actual pandemia

ha obligado a los centros escolares a disponer de una figura de referencia que en muchas ocasiones ha debido de ser ocupada por personal docente o administrativo sin la cualificación necesaria y sobre ellos han recaído decisiones como abrir y cerrar aulas valorar los síntomas de alumnos adaptar medidas sanitarias de prevención de aislamiento etcétera funciones para las que evidentemente no estaban preparadas y que han tenido que superponerse a sus responsabilidades habituales

ya implantada se hubiese evitado el caos la confusión y los retrasos

repito si no discutimos si no ponemos en cuestión el que en los centros laborales exista un servicio médico que

por qué en los centros escolares donde a veces hay un mayor número de personas y con mayores necesidades por qué esto no lo vemos claro

para una figura de este tipo es evidente que estas no pueden cubrirse con una atención parcial desde el centro de salud

bastante sobrecarga tienen ya las enfermeras de los centros de atención primaria como para encima cargar sobre sus hombros con responsabilidades y tareas añadidas es obvio que si lo vamos a intentar solucionar desde los centros de salud

una especie de parche para ir tirando no estamos hablando de esto estamos hablando de proporcionar desde el departamento de educación a cada centro educativo un profesional de enfermería

entre otras cosas porque es importante el lugar de trabajo es decir

las necesidades del centro porque entre otras cosas no se vive de forma directa la dinámica del centro no se trabaja allí no se conoce a fondo

haya una persona que haya una figura para la que la

primera y única prioridad y no se le preste atención únicamente cuando ocurre un incidente sino más bien que trabaje anticipadamente

por tanto no estamos pidiendo a las enfermeras quede claro que trabajen más que en los centros de salud

un nuevo mercado laboral en el que encontrarán interesantes oportunidades profesionales que ahora no existen para ellas y no es esta una propuesta con contenido político o al menos no la hemos hecho con esa intención no creo que tenga ninguna carga ideológica

y en las necesidades de los ciudadanos especialmente de los escolares decía

estoy convencido de que la figura de la enfermera escolar terminará abriéndose paso más pronto que tarde

se sensibilice adecuadamente la pena es que mientras estaremos perdiendo un tiempo precioso

creemos que mejora la salud de las comunidades escolares y creemos que ahorra dinero muchas gracias

del proponente respecto a la necesidad de un enfermero escolar en cada centro por supuesto opinión que comparte en parte con la que

el sindicato de enfermería satse también defiende la

con la premisa de lograr que todos se beneficien de la labor asistencial y defiende un modelo de enfermera escolar

que no existe ningún modelo de enfermera escolar ni privado ni público en este momento que sea una realidad usted hacía referencia

enfermero escolar pero sería bueno recordar también que se hizo porque en aquel momento no existía una sanidad pública que se pudiese denominar como tal era la selva y por lo tanto

que no eran todos enfermera escolar se convertían en una especie de salvaguarda

que era ningún tipo de atención sanitaria el modelo que propone el sindicato de enfermería

no está instaurado señor gil y no existe en ninguna comunidad autónoma en ninguna

y dependiendo de salud que es lo que plantean ellos y no de educación no existe es cierto que el concepto está algo más interiorizado en algunas comunidades se ha implantado casi de forma anecdótica porque las seiscientos enfermeras de madrid vienen a suponer el veinte por ciento de los centros escolares de la comunidad

y en este caso depende de educación no de salud como reclaman

en la comunidad autónoma de madrid como usted decía también en cataluña se ha hecho algún pinito y también en canarias

muy parcial y con otro modelo distinto y en cualquier caso yo entiendo que es una opción para los centros escolares pero entendemos que en nuestro caso no es la más conveniente de hecho en el país vasco este asunto está regulado desde el veintinueve de noviembre del dos mil cinco

de actuación para atender a la población escolar con necesidades sanitarias específicas a propuesta de los consejeros de educación universidades e investigación y sanidad y dentro de dicho acuerdo ya se preveía la creación de grupos de trabajo para elaboración de protocolos destinados al profesorado respecto a necesidades sanitarias en el contexto escolar y dispensación de medicación algo a lo que hacían referencia también tanto la representante de podemos como de bildu porque es importante también

y programas de educación para la salud según niveles educativos así como actividades de formación y asesoramiento en relación con determinadas enfermedades y en situaciones de urgencias

la asistencia de toda la población escolar y actúa por norma a través de los centros de salud

no tienen como tarea la asistencia sanitaria al alumnado salvo en casos

y existe además una serie de protocolos que permiten una rutina educativo sanitaria en casos urgentes mediante la colaboración voluntaria del profesorado previa delegación de autoridad expresa por parte del padre o tutor de cada escolar en situación sanitaria especial

en cada caso una vez conocido un problema sanitario del niño o niña el padre o tutor lo comunica a la dirección del centro

necesitar una medicación y la dirección del centro si no fuese capaz de dar solución con sus propios recursos se pone en contacto

quien arbitrará la medida operativa adecuada existe un protocolo específico para atención de urgencias sanitarias y existe un protocolo

que está también publicada y esto es un ejemplo de lo que viene ocurriendo de forma habitual en los centros escolares coordinación activa y permanente entre cada centro educativo y su centro de atención primaria más cercano

que es el mejor modelo y ese es el modelo por el que ha optado también el ministerio de sanidad y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas independientemente del color político que tenga cada una

reconoce que solo hay actualmente dos comunidades autónomas madrid y cataluña y parcialmente canarias que han optado por el sistema de implantación del enfermero escolar como decía antes si bien en las tres comunidades citadas la implantación lo ha sido de forma prácticamente simbólica y solo en algunos centros en la actual situación de pandemia entendemos que los servicios de salud pública se convierten en absolutamente fundamentales para afrontar la covid la mayoría de responsables políticos y sanitarios entienden

destinados a reforzar los servicios de atención primaria que constituyen el valladar más importante para luchar de forma eficaz contra la pandemia también en los centros escolares y por otra parte si algo ha quedado demostrado durante esta pandemia

menos afectados por problemas de contagios entre niños y profesores de hecho el tanto por ciento de aulas cerradas por este motivo lo ha sido en un porcentaje

el enorme esfuerzo que tanto los profesionales docentes como no docentes

para implementar todas las medidas necesarias tanto desde el punto de vista organizativo como de control

por la presentación de una enmienda conjunta que pone en valor el trabajo realizado por todos los centros escolares en euskadi y una adecuada coordinación de cada centro escolar

funciona ha funcionado bien porque se han dado casos y cuando una cosa funciona hay que explorar todas sus posibilidades sin lanzarse a aventuras yo no le niego

y que está funcionando y en todo caso lo que hay que reforzar son como decía los servicios de atención primaria de quien depende esa labor de coordinación a realizar con los centros escolares pensamos que es el que mejor sirve en estos momentos para optimizar recursos tanto educativos como sanitarios y afrontar del mejor modo posible la pandemia que padecemos por eso vamos a apoyar que hemos alcanzado socialistas y nacionalistas vascos y por supuesto lamentándolo mucho no apoyaremos la iniciativa que ustedes han presentado

funtsezko zutabeetako bati buruz ari garelako señor gil no puede comparar la sociedad de inicios del siglo pasado y sus necesidades

y más si cabe en medio de una pandemia mundial ya lo recoge el primero de los principios del programa de gobierno para esta legislatura la pandemia de la covid diecinueve un punto de inflexión respecto a las necesidades de salud de la población y prioridades de política sanitaria según patologías riesgos de salud y grupos sociales

y de gobierno en materia de salud a la luz de las nuevas amenazas experimentadas

la situación de emergencia ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de seguir profundizando en el cambio de paradigma iniciado hace más de una década uniendo lo sanitario

e incorporando la perspectiva de salud en todas las políticas eta guzti hau helburu izanik zelan jardun beharra dago zelan jarduten ari da jaurlaritza

ya establecido con el departamento de salud desde el año dos mil seis para la atención sanitaria especial durante el horario escolar eta bukatzera noa presidente andrea

esa necesidad de implementar la figura de enfermero enfermera escolar y por tanto tampoco la de convertir su figura como referente

esta crisis es que la coordinación con las osi con la atención primaria correspondiente funciona el sistema de salud pública en euskadi ha demostrado que tiene músculo suficiente y una estructura sólida

y seguir desarrollando el resto de cuestiones anteriores como la de atender a los centros

ni en legislaturas anteriores cuando iniciativas muy similares a esta

más conveniente seguir trabajando en colaboración con los centros de salud para atender

específicas de manera permanente se están haciendo protocolos específicos para mejorar la atención de determinadas enfermedades y su gestión ha comentado el protocolo de la diabetes el señor pastor y lo mismo con otros departamentos o entidades para dar respuesta a toda esa lista de funciones que el señor gil nos ha enumerado aquí se trata de trabajar en colaboración vuelvo a repetir de manera transversal

atrapadas en el tiempo así es como se encuentran las enfermeras que creen en la enfermería comunitaria como un servicio fundamental que el sistema de salud ha de prestar a la ciudadanía educación promoción de la salud contacto estrecho con la comunidad tareas

y que según comentan muchas de las afectadas tiene un carácter muy marcado voluntario atrapadas en el tiempo elevando reivindicaciones

desde vox hacemos una encendida defensa de la enfermera escolar

entre administraciones educativas y sanitarias una demanda que esta pandemia además ha convertido en urgente y que además hoy repito es de máxima necesidad

la escasez de profesionales de enfermería en españa y de forma muy especial en el país vasco y esto nos lleva a otra cuestión que se repite también en el tiempo esa exigencia de un determinado perfil lingüístico en euskadi un perfil que no cura

esto nos lleva a un callejón sin salida sabemos del papel que pueden jugar las enfermeras en los centros escolares fomentan la responsabilidad positiva del alumnado promueven la salud y la responsabilidad actúan ante problemas sanitarios reales y gestionan casos concretos más en estos tiempos de contagios y contactos estrechos pero también sabemos de la escasez de profesionales qué hacemos

hablen o no hablen euskera después este gobierno debería hacer una apuesta decidida por la enfermería comunitaria por reconocer nuevos roles a las enfermeras y por dotarlas de un merecido mayor protagonismo en nuestro sistema sanitario

del mucho trabajo que pueden realizar en nuestros colegios del servicio que pueden prestar a nuestros hijos y a la sociedad en su conjunto en esta cámara hablamos mucho de la educación

hay que tener en cuenta que cada vez hay más niños con diferentes problemas de salud y es bueno tener una enfermera que pueda atenderlos para seguir incidiendo en esta educación inclusiva dicho esto vamos a ver en qué escenarios nos movemos una pnl sensata que está condenada al fracaso

todos sabemos que bildu ni podemos van a respaldar jamás esta iniciativa por la imposición lingüística y los partidos que sustentan al gobierno van a sacar adelante su enmienda para que todo siga siendo como hasta ahora para seguir haciendo

articulando para seguir reforzando para seguir fortaleciendo palabras que a ellos les gusta mucho utilizar en todas sus enmiendas

que las demandas de los profesionales de los sindicatos de todos los grupos de la oposición carecen de sentido los docentes

docencia y los profesionales de atención primaria están sobrecargados y no tienen capacidad para absorber más carga asistencial procedente de los centros educativos

político que puede acarrear enormes consecuencias sanitarias sociales y económicas el tiempo dará y quitará razones y nunca

bueno contento estaré si conseguimos que como fruto de este debate estemos de acuerdo en que hay que reforzar

en los centros educativos algo es algo parece que hay que avanzar despacio la diferencia está en si esa mejora la hacemos

o si la hacemos desde los ambulatorios bueno pues lo dicho

es decir los ambulatorios se están limitando a hacer lo urgente lo imprescindible no yo hablaba de otra cosa yo hablaba de otro tipo de funciones que se las he enumerado una por una

así que lo que estamos diciendo es que no a eso no por supuesto por otra parte nos dicen no pero es importante incluir la formación de los padres también claro claro

los ambulatorios eh quiero decir que bastante tienen y más ahora

por qué todos aceptamos sin ningún problema que tiene que haber un servicio médico en un centro laboral y sin embargo nos parece

porque debe ser mi propia dificultad para entender el asunto

no alcanzo a entender la historia porque no estamos hablando de que el centro escolar sustituya

de esto no se trata se trata por el contrario de mejorar la colaboración de que las cosas se hagan mejor de que haya justamente un enlace de que haya alguien que se encargue

por tanto esto es complementario no es sustitutivo bueno

cuando voten que no que estamos diciendo que no a una propuesta

que no sé si quizá me he explicado mal antes cuando he contado la historia

sino precisamente para explicar que no es una iniciativa que se me ha ocurrido a mí esta noche sino que tiene realmente una larga historia detrás

es porque todavía no hemos llegado a ese nivel de madurez o a ese nivel de evolución y creo que en el futuro

de futuro es más en fin la vida da muchas vueltas y no sé

esta idea aquí estaremos los que estamos hoy aquí en el salón a lo mejor no no pero repito lo que no me parece de recibo es que lo que se diga es que no hay que hacer nada que ya está todo bien que con lo que hay es suficiente que tenemos dos protocolos por ahí para la diabetes y que es suficiente

no a la enfermera escolar no a avanzar

por lo tanto nos quedamos como estábamos gracias eskerrik asko gil jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

porque como decía antes nos permite hablar de salud nos permite hablar de salud escolar mucho más allá de todo lo que estamos aquí cada día cada día hablando

que es lo que quería decir antes en mi intervención lo que le he dicho y creo que lo he dicho bien claro no podemos aislar

se cocine todo lo que pasa no la escuela es una parte más de la comunidad en la que está insertada y entonces desde la atención primaria desde nuestros centros de salud

hemos ido juntos a visitas desde la comisión de educación hemos estado en las inspecciones

hemos estado en centros y hemos ido preguntando qué les parecía la figura del

es que nadie va a estar en contra de que haya una figura que de ese servicio pero

contratada exclusivamente desde el ámbito escolar como digo tiene que ser un enfoque comunitario los indicadores de la salud comunitaria están en los ambulatorios y al señor pastor

son las que he conocido en la etapa escolar de mis hijas eran colaboraciones con un ambulatorio de un pueblo el ambulatorio de la zona unas colaboraciones que fueron hasta

sí que tenían asignada esa tarea los equipos de atención primaria

esas colaboraciones existían pero a partir de dos mil dieciséis se les recortaron

exactamente veintiocho de julio bueno dos mil catorce osakidetza elimina el servicio de salud escolar en varias comarcas de bizkaia

concretamente y las he mencionado porque de verdad que las conozco las disfruté aprendí muchísimo de ellas y recuerdo con qué cariño mis hijas veían a su pediatra y a su enfermera en la escuela como una cosa habitual como algo habitual y lo vivíamos todas con esa naturalidad y

me alegra que sepan qué es lo que están haciendo porque es que si no supiesen que lo estaban haciendo

preguntasen a los centros preguntasen en los centros escolares realmente estáis sintiendo

según oímos es como que la asistencia se está dando yo digo desde lo que he vivido y desde las consultas que hago

un poco más allá del papel y de seguir reforzando seguir fortaleciendo competencias del alumnado a la promoción de la salud y demás se pregunte en los centros si esto está ocurriendo de verdad eta garde andreari

eskerrik asko porque yo creo que cada vez que se llega a un acuerdo siempre se aprende algo y yo en este caso tengo que reconocer que quitar

de nuestra enmienda de nuestra enmienda transaccional fue un aprendizaje porque

hay muchas otras figuras sanitarias que están en la atención primaria y que pueden dar este acompañamiento en las escuelas entonces eskerrik asko eta besterik ez

desde dónde abordar el debate en sí y

de parásitos capilares puede decir piojos no pasa nada todas hemos tenido y evidentemente no vamos a poner

no sé eta arrizabalaga

y funciona pues habrá que seguir por esa línea

sail edo entitate ezberdinekin colaboración yo creo que el señor gil también hablaba y creo que todos los grupos hemos hablado de colaboración porque compartimos totalmente el objetivo y esto

de lo mismo en todo momento solo que bueno no compartimos las formas y en este caso

que efectivamente este modelo es el más adecuado porque funciona y así ha quedado demostrado yo no sé si somos una sociedad lo suficiente madura aún señor

que funciona y que por tanto entendemos que tenemos que seguir apoyando y trabajando bederatziehun eta hogeita hamasei zentro ikastetxe ditugu

batera el estatuto del artista del estado es en definitiva una hoja de ruta legislativa

recoge una serie de medidas que supondrían una mejora en el sector y en el caso de algunas cuestiones de las que desgraciadamente no tenemos competencias para regular y lo valoramos positivamente porque todo lo que supongan mejoras para un sector

es algo positivo venga de donde venga pero si bien eso es cierto también lo es que se queda cojo ya que no atiende a la realidad de nuestro ecosistema cultural o lo hace de manera parcial

por eso es necesario el estatuto propio pero además entre las cuestiones que sí han sido recogidas que sí repercuten directamente aquí también hay que aterrizarlas a nuestra singularidad a nuestra realidad estamos hablando de que

el primero de los apartados de este estatuto son propuestas y recomendaciones en materia de fiscalidad rendimientos irregulares tipos impositivos exenciones deducciones de gastos retención a cuenta del irpf de rendimientos de escaso importe

y procede por lo tanto su adecuación ampliación en algunos casos y posterior aplicación el siguiente punto de dicho estatuto son las propuestas y recomendaciones en materia de protección laboral y seguridad social

desgraciadamente no podemos hacer demasiado más allá o por lo menos en el corto plazo en el corto plazo más allá de seguir reclamando después de cuarenta y uno años que tiene bemoles

pero sí que nos corresponde gestionar las políticas activas de empleo y en materia de protección y salud laboral tenemos competencias también y podemos hacer mucho y es que podemos y debemos hablar y codecidir entre los agentes culturales

y qué decir sobre la materia de representatividad sindical de promoción de la capacidad de interlocución del tejido asociativo mucho por escuchar mucho por hacer mucho por construir

es la enfermedad crónica que el sector cultural ha venido padeciendo desde hace años y por obligación

pues la realidad del mundo del arte y del ecosistema de la cultura es sumamente frágil y necesita de medidas que incentiven tanto su mantenimiento como su crecimiento en condiciones dignas precariedad e incertidumbre son las características más destacadas y preocupantes de la situación laboral de los artistas técnicos o montadores en euskadi

que sea necesario afirmar que los creadores quieren poder vivir de su trabajo pues el arte y la cultura también es un trabajo

pero como tal bajo esta concepción de cultura como trabajo

los artistas y los oficios conexos no están pidiendo privilegios ni tratos de favor

y después de realizarlo y de contribuir a esta sociedad con su arte lo que piden a cambio

el pasado mes de noviembre los grupos parlamentarios aquí presentes declaramos a la cultura como un bien de primera necesidad para esta sociedad

para poder seguir avanzando y reinterpretándonos ahora bien desde nuestro grupo parlamentario también entendemos que la cultura

el ecosistema cultural también está formado por quienes lo realizan y dan forma a estas creaciones

y no es acaso igualmente imprescindible los trabajadores que hacen posible estas obras

por qué no les dotamos de las medidas necesarias para poder desarrollar su trabajo como es su derecho porque otra cosa está clara no habrá cultura si la sociedad no puede acceder a ella

en estos momentos hay que tener en cuenta una de las características excepcionales del trabajo en el sector cultural es la llamada intermitencia ya sea trabajador autónomo trabajador por cuenta ajena la intermitencia es la situación que les lleva a trabajar de obra a obra de forma puntual

en el mundo de la cultura la normalidad laboral simplemente no se da

lo que les mantiene totalmente desprotegidos y con la imposibilidad de acceder a los derechos

todo esto quedó claro en la legislatura pasada en el congreso de los diputados

y cómo esta fue aprobada y validada por todos creemos

fue la de superar la división tradicional del ecosistema cultural y centrarse

de todos ellos los derechos laborales fiscales y sociales el avance que supuso el informe de esta subcomisión fue posible gracias a la escucha de todos los actores allí implicados con la cultura y el poder hacerse eco de sus reivindicaciones algunas de estas reivindicaciones ya las conocíamos como la simultaneidad de la jubilación y los derechos de autor pero otras situaciones laborales eran más desconocidas y fue en aquel momento cuando se visibilizó la labor por ejemplo de los técnicos o de los ayudantes

y que a la vez son indispensables para que disfrutemos de esas obras de teatro de esa exposición o de ese concierto es cierto que aunque hay mucho camino por recorrer

una hoja de ruta clara que sería el informe de la subcomisión

y la necesidad de mejora ahora toca recoger lo aprendido

pues bien creemos que desde la comunidad autónoma en nuestro marco normativo y en nuestro marco competencial se pueden dar pasos significativos para avanzar en la búsqueda de este estatuto

en el marco de fiscalidad protección laboral y protección social también hay que decir que todas las medidas que se recogen en el informe del estatuto del artista no son necesariamente del ámbito legislativo la transparencia y las buenas prácticas a la hora de la contratación también es una reclamación constante en el sector y creo que ya es hora también de perseguir a falsos autónomos o los desequilibrios en la contratación

nuestra enmienda es una idea que ya he expresado en esta tribuna en más de una ocasión creemos que es una iniciativa realista

la creación de una base de datos dependiente de lanbide donde los artistas trabajadores del mundo de la cultura puedan reflejar su vida laboral sin necesidad de estar inscritos

ayudará mucho a tener un mapa completo del ecosistema cultural articularía el sector y será una herramienta en la cual apoyarse a la hora de que los diferentes agentes del sector cultural interactuaran entre ellos o la administración con estos mismos agentes

en definitiva se avanza hacia esa profesionalización del sector que tantas veces hemos dicho no quiero marcharme de la tribuna sin agradecer al señor estarrona que haya incluido nuestra enmienda en su iniciativa original y tampoco sin dar las gracias

que están en el palco gracias por su trabajo y ánimo con su lucha no me cabe duda de que será en beneficio de todos muchas gracias eskerrik asko angulo jauna

gracias señora presidenta consejera señorías invitados buenos días a todos bien señor estarrona comparto con usted desde luego la inquietud y yo también le agradezco

poner sobre el trabajo de este parlamento y del gobierno lo que es necesario hacer y le agradezco la iniciativa mi grupo entiende que el gobierno vasco

debe de ser quien hoy mismo ya se ponga a trabajar en la exigencia generalizada

el espectáculo a sus profesionales trabajadores creadores en consonancia con otras iniciativas que usted bien ha recordado aquí está claro

y del trabajador de la cultura ya hemos tenido en el parlamento tanto en comisión de cultura como en los contactos que los grupos tenemos con los profesionales con el mundo cultural del arte y los espectáculos hemos visto la necesidad de ordenar muchas situaciones profesionales que hoy se mueven en una inseguridad jurídica en una seguridad económica laboral

más que ver también cómo los medios de comunicación en el sentido en el que han dado a las comparecencias parlamentarias que hemos tenido pues para darnos cuenta de que la situación

de crisis importante en ese mundo y que hay que tomar medidas efectivamente en el congreso

de crisis sanitaria o social se ha puesto además de manifiesto en mayor medida la precariedad de este colectivo y por ello

institucional que despeje el futuro de la profesión de la mejor manera posible este es el momento o sea que

hay que trabajar y hay que instar a los gobiernos a los ejecutivos a que lo hagan por ello son importantes muy importantes las conclusiones y recomendaciones de la subcomisión del congreso pero al final

deben de tener aún el recorrido que el ministerio de cultura o los ministerios diversos del ministerio de cultura de hacienda o de trabajo les puedan dar y eso aún no se ha producido y también eso es inquietante porque hay que trabajar y

y esperamos que se haga pronto y además esas recomendaciones conclusiones quedan pendientes en esas mismas

cuando se ve que las regulaciones es necesario abarcarlas si se refiere a una serie de ámbitos concretos

habla de la seguridad social de los derechos de autor efectivamente de los temas fiscales

algo falta y por eso mismo hay que ponerse las pilas aquí de una manera esencial en ese papel

en este caso de la comunidad autónoma vasca incluso de los territorios forales en su papel de ordenación profesional en ese sector nosotros entendemos que el programa de gobierno de la doce legislatura presentado por el lehendakari con los grupos

en su compromiso ciento doce del capítulo dieciocho cultura euskera y deporte configura lo que tiene que ser configura digo con el marco de lo que tiene que ser el estatuto del artista y del trabajador cultural pero eso hay que hacerlo hay que negociarlo hay que enfocarlo hay que darle contenido

al parlamento para que lo hablemos en ese programa gobierno de la doce legislatura en el artículo

donde se tiene que enmarcar aquí teóricamente el papel y lo que tiene que ser el estatuto

incidiendo en la mejora de sus condiciones laborales y su profesionalización efectivamente y luego

mantener y actualizar el apoyo público a la creación producción de la cultura impulsando especialmente la cultura en euskera el empoderamiento de las mujeres ahí está una de las claves

de los y las profesionales de la cultura ahí está la clave adaptando la normativa fiscal a la singularidad del trabajo cultural está bien claro que esto hay que hacerlo en otro ámbito no va a ser en este parlamento ni este gobierno pero hay que enfocarlo

definir y acordar o implementar los códigos de buenas prácticas en la contratación

impulsar la validación del recorrido profesional de los y las profesionales de la cultura en creación mediación y aspectos técnicos de cara a la aportación

o incentivar la formación en gestión de trabajadores y trabajadoras y micropymes del sector cultural en colaboración con otros departamentos

darle contenido está bien y eso es lo que estamos pidiendo en este momento

este marco llenarlo de contenido y negociarlo con el sector con los sectores

bastante heterogéneos y de los trabajadores culturales

tienen mucho que decir mucho mucho que decir en relación con las repercusiones fiscales de la ordenación de las profesiones en este caso de la cultura y del espectáculo en concreto el punto dos de las conclusiones tiene

forales en fiscalidad o sea eso no se puede hablar de lo que puede ser una guía lo que surja de la ordenación que haga

y negociar nosotros también en las instancias forales yo entiendo que es fundamental que el gobierno de españa regule pronto lo contemplado

es necesario que lo regule pronto no sé qué parálisis existe en este momento las recomendaciones de la subcomisión parlamentaria se aprobaron por

estábamos de acuerdo en esa comisión no es un paso importante

parlamentaria el primer paso lo han dado los profesionales agrupándose haciendo sus estatutos sus

sus comparecencias parlamentarias y esa labor efectivamente

principio de buena noticia y a renglón seguido es el gobierno vasco por ellos no han por eso se han interesado es decir

labores y eso nos tiene que afectar a nosotros que el señor zupiria elabore ese documento venga

y por eso nosotros hemos presentado una enmienda que consideramos

primero a la labor del gobierno con el parlamento

que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que elabore como comunicación de gobierno está bien claro la comunicación tiene unas características especiales de debate luego en este parlamento

que ya hemos visto que lo ha enmarcado en su programa de gobierno así que ahora lo tiene que negociar completar y llenar de contenido que tenga en cuenta la participación del sector y que lo envíe a la cámara a lo largo de dos mil veintiuno o sea comunicación para su debate

en el órgano que corresponda en este parlamento para nosotros lo más importante ahora es la actuación de los ejecutivos de españa y a renglón seguido del vasco que se haga ya hemos puesto la fecha

presente algo sólido porque es una exigencia

pues bueno ya ya la ponencia ya dejó sus propuestas es decir el hecho de lo que tiene que pasar ya se habló

valen desde luego para todos están ahí yo creo que esa fue valen para todos los trabajadores de las comunidades autónomas vinculadas a nuestro ordenamiento jurídico yo creo que esa esa por eso quiero decir una ponencia más podía ser interesante pero yo creo que lo que hay que hacer es de urgencia es que

ese proyecto nosotros seguiremos atendiendo en la comisión como lo hemos hecho

con varios colectivos seguiremos atendiendo a los colectivos de artistas pero entre tanto el que tiene que trabajar es el gobierno

sobre la necesidad especial en tanto que somos vascos de tener un plan distinto en país vasco en burgos en santander

divide y vencerás y en eso por supuesto vox no va a estar el creador cultural

al uso en tanto en cuanto su trabajo su quehacer es completamente distinto al de cualquier otro sector no es un procedimiento fácilmente cuantificable

al resto nuestro objetivo debe ser ayudar pero ayudar con mayúsculas y les puedo asegurar que para esto da igual en qué punto de españa se ubique la empresa la diferencia esencial radica en saber qué entendemos por ayudar unos y qué entienden por ayudar otros

pero lo usan como eslogan en el fondo desprecian la cultura pues solo defienden

defienden un tipo muy concreto de cultura aquella que más rédito político

pagar a aquellos que digan lo que ustedes quieren escuchar esa es la cuestión esto es en lo que quieren hoy abundar y es de lo que no se entera muchas veces el partido popular trabajan en la justificación de un relato falso ayudan a unos artistas concretos y se olvidan de los demás solamente potencian los proyectos que dicen lo que el nacionalismo quiere decir

en una agitador político a favor de su causa dónde queda entonces

y dónde acaba la política en vox entendemos el asunto de otro modo creemos

y creemos que nuestro trabajo no es dirigir al artista limitarlo y conformarlo

creativa sin abrasar por ejemplo a impuestos ni a los creadores ni a los consumidores y dejando que sea la propia sociedad civil la protagonista cómo

grande fuerte y que haga atractiva la inversión en asociaciones fundaciones o proyectos culturales y para esto no hace falta un plan específico

algo que lleva faltando en esta región desde hace ya varias décadas eskerrik asko martínez andrea

bai mahaiburu andrea eguerdi on guztioi bueno iba a empezar diciendo que parecía que había un consenso por lo escuchado hasta ahora desde luego

no creo que vayamos a tener ningún consenso con todo lo demás dicho yo creo que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa desde luego pero me gustaría comenzar mi intervención reconociendo el gran papel que juegan los agentes de nuestro ecosistema cultural en tantas y tantas facetas de nuestra vida desde el ocio

o a la construcción de nuestra identidad comunitaria porque yo sí creo que la cultura crea identidad el sector cultural es mucho más que una mera actividad económica que debemos proteger es

nuestro anhelo de futuro nuestros sueños y nuestras esperanzas es por ello preciso cuidar a quienes trabajan en cualquiera de las diferentes facetas de la cultura

es el reflejo de una sociedad que no está sabiendo cuidar uno de sus mayores tesoros de alguna manera incluso me atrevería a decir que la salud de una sociedad se puede medir observando la salud de su cultura es por ello que uno de los compromisos políticos que suscitó mayor unanimidad en el congreso de los diputados

se ha repetido por casi todos los grupos que han intervenido y este es el primer punto que quisiera subrayar y que también lo han hecho otros grupos el consenso a mediados de dos mil dieciocho todos los grupos con representación en el congreso de los diputados puso en marcha una subcomisión para diseñar

fue un trabajo intenso también se ha dicho con más de treinta comparecientes y de todos los sectores las conclusiones

por unanimidad insisto una vez más en la cuestión del consenso y la unanimidad

tanto para el actual gobierno vasco como para el gobierno de españa es estratégico y es parte del programa de gobierno acordado entre el partido socialista obrero español y podemos a nivel nacional eso sí a nadie se le puede escapar que se trata de un trabajo complicado me consta que ya han comenzado los trabajos interministeriales necesarios

que por su transversalidad será compleja y requerirá

pero se está trabajando en ello y estoy convencido de que verá la luz bastante antes de que finalice la legislatura

es claro firme y decidido entonces qué es lo que nos impulsa a votar en contra de la proposición no de ley

eh bildu en primer lugar porque no entendemos qué necesidad hay de replicar el trabajo que ya se ha realizado los socialistas no vamos a repetir un camino por el que ya hemos transitado

por unanimidad las conclusiones del informe de la subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista el camino a seguir por tanto

no tiene ningún sentido perder ahora un tiempo valioso duplicando esfuerzos para llegar a las mismas conclusiones pero también en segundo lugar por una cuestión competencial

más de la mitad hacían referencia a legislación básica para cuya modificación no tenemos competencias en este parlamento así entre las recomendaciones de aquel informe se habla de la necesidad de ampliación y adaptación de los mecanismos de cobertura social de los artistas y las artistas a la nueva realidad productiva

y auxiliar se habla también en ese informe de la necesidad de adaptar la norma de cara a mayor protección en caso de maternidad

de la necesidad de adaptar la condición de sindicato más representativo para que el sector sus trabajadores y trabajadoras puedan negociar sus propios convenios colectivos así como acuerdos de carácter vinculante

para desarrollar las mejoras de la cobertura y el acceso a los trabajadores y trabajadoras autónomas a las prestaciones ya existentes por cese de actividad maternidad paternidad lactancia riesgo de embarazo enfermedad o accidente de trabajo también se habla en ese informe de la modificación del real decreto catorce barra treinta y cinco de mil novecientos ochenta y cinco

de temporada así como incentivar su transformación en indefinidos también se habla en ese informe

para ampliar la categoría de enfermedades profesionales extendiendo la cobertura y vigilancia de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras de dicho sector como ven sus señorías

la parte más sustancial de las mismas son competencias plenas del estado

estatuto de trabajo autónomo ley general de seguridad social ley de prevención de riesgos laborales así como los diferentes decretos y alguno más

en el congreso de los diputados es allí donde está ahora mismo el debate porque este trabajo previo es absolutamente necesario sin estas modificaciones

sería poco más que un ejercicio cosmético porque los socialistas no cerramos la puerta

pero este deberá ser consecuencia de las modificaciones previas en la normativa básica ya señalada sobre esa base es evidente que tendremos que seguir trabajando juntos el gobierno vasco

pero también es fundamental que se siente a hablar con diputaciones ayuntamientos y demás agentes concernidos porque tendremos que adaptar también nuestras normas usted lo ha dicho

a la especificidad de nuestro sector estoy pensando todos lo hemos dicho en la fiscalidad pero es preciso empezar por la estructura del estatuto

sin negarle ninguna importancia a los trabajos que se tengan que realizar desde el gobierno vasco las bases

están vinculadas a las necesarias reformas de buena parte

también quisiera detenerme ya para finalizar a explicar el sentido de mi voto o de nuestro voto a la enmienda presentada por el partido popular ciudadanos señor barrio y antes hemos hablado estoy convencido de que su grupo suscribe todo lo expuesto hasta ahora

pero la ambigüedad de su enmienda nos impide votar a favor de la misma para nosotros es fundamental que quede claro cuál es el camino que se tiene que seguir con sus diferentes etapas estoy convencido además de que son matices que ustedes comparten pero no acaba de quedar claramente explicitado en su enmienda estamos de acuerdo como he dicho en que una vez puestas las bases normativas a nivel nacional habrá que adaptarlas

a la realidad y especificidad de nuestro sector ya lo he explicado entendemos que su enmienda iría más enfocada a esa segunda fase del proceso una vez que ya se tenga el estatuto

sin embargo como he dicho la ambigüedad del texto no acaba de dejarlo claro por eso mi grupo se abstendrá en la votación de dicha enmienda nada más muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea bueno y de pequeña a mayor sin entrar a debatir con quienes consideran que matar toros es arte señor barrio

enmienda vincula la labor del gobierno con el propio parlamento pero es que nosotros y nosotras lo que buscamos es que la labor también del parlamento esté vinculada directamente a los agentes culturales y

darles voz en todos los debates para que puedan ser partícipes

la sana costumbre de hacer política también con relación a todos y todas las agentes o al mayor número posible de agentes sea del sector que sea porque es una forma de hacer

hacía falta cierta urgencia y que una ponencia nos podía dilatar hombre en su enmienda también

de las percepciones de la necesidad no y del tiempo y de alguna manera señor alonso está bien que usted haga un reconocimiento

más que un reconocimiento lo que hay que hacer es abrirles abrirles espacios abrirles espacios de diálogo hacerles espacios para que puedan llevar a cabo un ejercicio

aportaciones sin que estén tuteladas por ningún representante político

a la enmienda no tan compartida tal y como usted ha dicho que hace el partido popular

todas las cuestiones y las competencias que tiene el estado y las pocas que tenemos aquí de legislación orgánica ha vaciado usted la cartera a la señora mendia la vicelehendakari segunda eh porque

la señora mendia no tiene nada que hacer según usted no tiene nada que hacer en este país

pero si usted coge el estatuto de los artistas y empieza a leer todas las medidas que se proponen en el mismo se dará cuenta de las setenta y tantas medidas que se plantean en cuántas

tenemos que traerlas y aterrizarlas a nuestra realidad y en cuántas tenemos las competencias propias para desarrollarlas y no son pocas de verdad

tanta necesidad al respecto y creo que no es tanto una cuestión

a culminar pero bueno simplemente

lidergoa gauzak modu partekatuan eraikitzeko ahalmena da el liderazgo es la capacidad

y colectiva lo otro es una especie de ejercicio de poder

que sí en parte la tiene pero no es una forma a nuestro entender correcta

la urgencia que ahora mismo está pidiendo el mundo del sector del arte no es tanto

la urgencia que está pidiendo ahora es la de salvar este año covid y el que todas las ayudas covid lleguen

con los interlocutores del arte con los interlocutores de la cultura pues esas ayudas hubieran llegado a todos

al sector de la intermitencia a los trabajadores por cuenta ajena intermitentes los han dejado en el camino al igual que han dejado en el camino a los trabajadores que tienen que compatibilizar su trabajo en el mundo del arte con cualquier otro trabajo para poder subsistir pues la intermitencia es intrínseca al arte es intrínseca a la creación desde el momento en que se creó

de forma constante tiene que tener períodos de investigación y períodos de relajo y en estos períodos para solventar estos períodos es para lo que se implementa el estatuto del artista el estatuto del artista tiene urgencia pues se viene hablando desde la época de zapatero del estatuto del artista o sea ya llevaba unos cuantos años y se eligió el método de la subcomisión

intervenir en el parlamento en este caso en el congreso de diputados y les daba voz por eso se eligió el método de la subcomisión

había otras propuestas pero bueno gracias en este caso al psoe y a unidas podemos se llegó a la subcomisión

el marco está claro señor el marco está claro el marco de ayudas que venimos hablando hemos hablado en muchas ocasiones

nuestros programas electorales el del programa de gobierno lo que se está discutiendo es el cómo y evidentemente en nuestra forma en la forma que hemos planteado el cómo es que primero se escuche

y desde sus necesidades desde su propia formación se aplique luego en la normativa no al revés por eso nosotros también vamos a votar en contra de la iniciativa del señor barrio

convertir en protagonista del debate porque yo lo que venía era a ayudar con mi enmienda está bien claro que no parece que lo voy a conseguir pero en cualquier caso lo primero decirle a la señora martínez que yo también estoy hablando de libertad es decir eso buscamos para los trabajadores de la cultura que hoy la ven limitada por una situación económica penosa y por las características de su lamentable situación

aprobada en relación con las recomendaciones por todos los grupos no estamos hablando en esta iniciativa que nos ha traído el señor estarrona no estamos hablando de la política cultural del gobierno vasco en relación con sus obsesiones y con algunas cuestiones con las que nosotros somos muy críticos nosotros lo que estamos hablando es de los trabajadores de la cultura

sea el que tenga las mejores condiciones el artista y el trabajador que se mueve alrededor

tenga las mejores condiciones para ejercer precisamente esa libertad esa libertad que también es la mía o es la nuestra o sea que en ese sentido y aquí además

la necesidad jurídica de hacer también nuestro trabajo las instituciones tienen que hacer también su trabajo si queremos que la regulación española que venga no sea incompleta es decir si queremos que no sea incompleta la regulación tendremos que hacer nuestro trabajo porque aquí hay factores decisivos a la hora de favorecer el trabajo

de los creadores y de los trabajadores de la cultura en ese sentido está claro que por eso mismo nosotros hemos aportado hemos tratado de ayudar

primero que lo tiene que regular el gobierno de españa tiene que hacer su trabajo no creo que sea ambigua mi posición yo creo que es clara porque yo lo que

cuando el gobierno recoja lo que el real decreto diga y haga su parte de trabajo el gobierno vasco lo traiga al parlamento como una comunicación yo creo que está clara que ambigua no es y señor estarrona y señor angulo

una posibilidad o un instrumento que puede ser una ponencia si podemos hacer ese trabajo todos los días si nosotros somos grupos parlamentarios

primero podemos llamar a los agentes de la cultura a los colectivos que tengan algo que decir ellos mismos saben también como

de cultura del parlamento vasco ilustrarnos informarnos

como se ha venido haciendo e ir trabajando a la espera de ese documento definitivo no me diga que se opone dos mil veintiuno bueno pues dos mil veintiuno

sabiendo que todavía quedan algunas regulaciones por completar que son las del gobierno de españa es un espacio lógico

que en el marco del compromiso que tiene el gobierno vasco que ya lo he leído antes de articular un estatuto

en ese capítulo dieciocho en ese compromiso ciento doce está claro que hay que hacerlo y que lo puede hacer pues ponemos un marco temporal de dos mil veintiuno para que lo haga oye ojalá lo hiciera antes pero igual el hecho de que usted no apruebe esta comunicación en dos mil veintiuno

así que yo creo que oponiéndose usted a este instrumento que yo le pongo sobre

no se sienta comprometido a traerlo en dos mil veintiuno y venga después nosotros

esfuerzo ahora el gobierno

que el marco de la comunicación estaba bien es posible que les haya sugerido también a los grupos que apoyan al gobierno

que venga en forma de comunicación yo creo que iba a acertar el gobierno trayéndolo así

en esas materias porque hay materias para trabajar independientemente de lo que haga el gobierno central

el estatuto no está en entredicho lo que hay que ponerse es a trabajar es decir yo creo que

siguiente grupo yo también voy a intentar responder de abajo hacia arriba

está ya en tablas señor angulo la urgencia del mundo del arte yo no sé si está o no en el estatuto del artista

es en el orden del día de hoy y es lo que hemos venido a debatir hay otras urgencias posiblemente pero bueno esa era la que estaba en el punto del orden del día señor estarrona no voy a entrar en algunas cuestiones porque sabe usted que hay una diferencia en las competencias entre gestión y legislación o sea

y créame que en cuanto al departamento de la señora mendia ese departamento tuve la suerte de trabajar en la legislatura anterior y de gestión se puede hacer mucho y muy bien

por aclarar un poco las tres fases en las que el grupo socialista

del estatuto del artista porque yo creo sinceramente que estamos debatiendo sobre cosas muy similares

realmente cuando hemos recibido a los diferentes colectivos que han venido a hablarnos de la dureza en la que se encuentran actualmente

nosotros hemos venido hoy aquí a hablar de problemas estructurales hemos terminado haciendo una especie de variaciones sobre un mismo tema y ese tema está recogido

por eso para nosotros el diagnóstico ya está hecho a partir de ahí es preciso comenzar a construir unos cimientos unos firmes que resistan lo que construyamos el edificio que construyamos encima y esos cimientos son el estatuto del artista a nivel nacional por qué

donde asentar esos cimientos esa excavación es la modificación de una serie de leyes de ámbito nacional unas leyes básicas que no podemos modificar desde aquí

porque es fundamental si no tenemos bien puestas esas zapatas si no construimos ese cimiento esos cimientos firmes a nivel nacional

castillos en el aire es preciso por tanto tener esos cimientos segunda fase

hay que tabicar para eso esa es la función ese es el estatuto básico del artista

cimientos resistentes será función del gobierno vasco hablando con los diferentes agentes que son muchos desde no solamente el colectivo obviamente el primero de ellos sino que también diputaciones ayuntamientos y otros agentes

adaptando esos cimientos a la realidad a la especificidad de nuestra cultura

pero insisto es fundamental tener buenos cimientos tabicarla porque para eso sí tenemos ladrillos y tenemos cemento que son nuestras competencias pero han de estar encajadas en esa estructura

una vez que tengamos todo esto montado tengamos cimientos

sólidamente estructurado habrá que dejar que el sector de forma autónoma sea capaz de negociar sus propios convenios colectivos y acuerdos vinculantes

exponer durante mi primera intervención si no lo hacemos en ese orden el edificio

claro que tenemos competencias pero las fundamentales las que nos van a dar la resistencia y el refuerzo están con competencias legislativas en el congreso de los diputados

que no solamente es una cuestión competencial para los socialistas también es una cuestión ideológica porque nosotros consideramos que esos cimientos han de ser comunes para todos han de ser unos cimientos firmes que amparen a todas las comunidades autónomas luego cada una de ellas que vaya adaptándola a su especificidad por eso es tan necesario que este primer debate en el congreso de los diputados no sé si me he explicado y esa es la razón por la que nosotros dividimos y somos tan insistentes en esos tres niveles y en esa secuencia ordenada de los hechos

la creación de un nuevo plan renove para la automoción en euskadi

primero por economía por la economía vasca segundo por el medio ambiente tercero por seguridad por seguridad vial

por la necesidad de ayudar a ciertos colectivos que han quedado especialmente vulnerables en la pandemia del covid en primer lugar el sector de automoción no es un sector cualquiera para nuestra economía vasca es un sector estratégico compuesto por más de trescientos empresas que facturan más de dieciocho mil millónes de euros y que dan empleo en nuestra comunidad

y aunque es verdad que un plan renove no implica que los nuevos coches vendidos se fabriquen necesariamente aquí

por otro lado una de las grandes transformaciones a las que nos enfrentamos y que está debajo de esta

es la tendencia a la electrificación del transporte

al modelo de los combustibles fósiles todavía tenemos que seguir progresando en la tecnología de almacenamiento de las baterías que todavía está un poco verde

pero parece que la tendencia es clara e imparable sobre todo porque no tiene muchas alternativas los detractores de la tecnología de la electrificación podrían ser los defensores del modelo del hidrógeno si podemos considerar que hoy por hoy todavía hidrógeno no parece viable para el vehículo privado

sea sustituida con lo cual seguramente tendremos todavía mucho tiempo

y de eficiencia energética sin embargo la realidad del parque automovilístico hoy es muy diferente no es esta

el nivel de electrificación como todos ustedes saben todavía es muy escaso debido sobre todo a que estos modelos son todavía muy caros la foto de la situación actual en euskadi es la siguiente

de este año este pasado febrero mil seiscientos veinticinco vehículos de combustión frente a los dos mil setecientos ochenta y uno vendidos en enero hemos tenido una caída del cuarenta y uno coma cincuenta y siete por ciento

en el resto de españa la media nacional de la caída ha habido caída también pero la media de la caída es del treinta y ocho coma cuarenta y uno una diferencia sustancial

en febrero de este año en euskadi se matricularon ciento tres vehículos eléctricos

el ritmo de crecimiento de las ventas de este tipo de vehículos en españa crece crece a un ritmo del diez coma noventa y tres y aquí como pueden ver no solamente no ha crecido sino que ha decrecido un poquito

un estudio de la organización de consumidores de dos mil diecinueve señalaba que el quince por ciento

en este momento no tenían la etiqueta de la dirección general de tráfico sobre emisiones debidas a su antigüedad

ese quince por ciento representaba el cincuenta por ciento de las emisiones de dióxido de nitrógeno controladas en euskadi no tenemos estudios al respecto pero no es difícil estimar

las causas de esta situación seguramente serán múltiples pero hay tres que son bastante claras y que son importantes uno la crisis económica del covid que hoy tiene la culpa de casi todo ha llevado a los consumidores también a inclinarse por la compra de vehículos de ocasión porque son más baratos

la falta de ayudas públicas al agotarse el día dos de septiembre los fondos para el programa renove de vehículos de euskadi es decir estamos desde el día dos de septiembre sin plan renove y tercero otro factor nada desdeñable

debido a la aplicación de la nueva normativa europea de emisiones en plena pandemia lo cual ha supuesto un incremento del cinco por ciento sobre el precio medio de un coche

en el peor momento pero bueno también es verdad que esto había que hacerlo necesariamente

se hace necesario atacar el segundo por ello consideramos que son necesarias ayudas públicas

hasta que el precio y las prestaciones de los vehículos eléctricos alcancen importantes mejoras de competitividad la tercera razón por la que defendemos esta propuesta hemos dicho que es por seguridad vial y creo que es evidente que

está en relación causal y directa con el número de accidentes

o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes incurridos con vehículos de diez a quince años de antigüedad en relación con vehículos de menos de cinco años

la dirección general de tráfico en comparación con los turismos de hasta cuatro años el riesgo de fallecimiento

y dos coma dos veces superior en los turismos de quince a diecinueve años un estudio realizado por la comisión europea en el año dos mil seis

y marcas de automóviles durante varias generaciones llegando a la conclusión

recordemos que una generación de vehículos son dos años el riesgo de lesión grave o mortal se reduce en un cuarenta y seis a un sesenta y cinco por ciento la subdirectora de estadística de la dirección general de tráfico explica la razón dice

algunos obligados por la normativa que han supuesto un menor riesgo de resultar gravemente herido o muerto en accidente de tráfico es evidente que

un coche nuevo incide directamente en incrementar la seguridad y esto creo que es un dato claro y cuarto

por la necesidad de ayudar a ciertos colectivos vulnerables que han quedado expuestos por la pandemia y me refiero en concreto a dos colectivos que se sienten especialmente perjudicados por la falta de ayudas a la hora de renovar el vehículo

en muchas ocasiones además para ello resulta imprescindible paralizar la actividad laboral son los autónomos

por otro lado los autónomos y pymes ya maltratados y especialmente perjudicados por la crisis económica del covid

del coche del vehículo no es para ellos un medio de desplazamiento sino que en muchos casos es una condición imprescindible para realizar su actividad laboral se convierte el coche para ellos por lo tanto

quirófano para un médico un ordenador para un informático es una herramienta de trabajo medios sin los cuales simplemente no pueden hacer su trabajo

les obligan a hacer gastos que les afectan gravemente a sus economías el caso

es un ejemplo paradigmático pero también el de un fontanero o el de un electricista o el de un camionero

con más plazas que son evidentemente más caros cuando además son las familias que tienen más necesidades económicas por ello entonces por razones económicas por razones de protección del medio ambiente por razones de seguridad vial y por razones de protección a estos colectivos vulnerables proponemos primero

que incentive la compra de vehículos electrificados sin olvidar también la necesidad de renovación de la flota existente con tecnologías actuales tanto diesel como gasolina porque todavía los vehículos eléctricos son muy caros todavía la infraestructura necesaria etcétera dos

ya que en su caso la adquisición de un nuevo vehículo se considera una actividad necesaria para poder realizar su actividad profesional y tres

especial consideración con las familias numerosas pero me temo que lo que va a pasar ahora es que los grupos que apoyan al gobierno votarán también negativamente esta propuesta y sin embargo me temo que en las próximas semanas

y eso que este es uno de los temas que el lehendakari nos decía que teníamos en común y que podíamos colaborar al respecto en fin luego dirán lo de la mano tendida y la colaboración en fin

eguerdi on nosotros pensamos que nos encontramos ante una iniciativa

sino porque pensamos que es una propuesta que vuelve sobre las mismas recetas que se han desplegado una y otra vez en las últimas décadas

en el momento actual uno de los más complejos de las últimas décadas en el que coexisten una potente crisis económica una crisis sanitaria sin precedentes

ustedes insisten hoy en proponer como solución la idea de subvencionar la compra de vehículos privados sin tan siquiera abandonar la idea de subvencionar

asumimos que nos encontramos ante una paradoja en relación al sector automovilístico en euskadi nadie puede negar y desde luego nosotros no vamos a negar la importancia

en el crecimiento económico de nuestro país y en la generación de empleo de calidad sin embargo somos conscientes también y a nadie se nos debe escapar el impacto nocivo que el uso del vehículo de combustión

y sus efectos sobre el cambio climático si el objetivo es abordar esa paradoja y desde luego para nuestro grupo

un intento de empezar a caminar hacia la resolución de los dos retos que mencionaba nos parece que la propuesta del grupo popular ciudadanos pues camina en la dirección equivocada en primer lugar como decía porque no cierra la puerta al enésimo plan renove para vehículos privados contaminantes de gasolina

y del cambio climático no pueden basarse solamente en sustituir coches diesel por coches eléctricos en una proporción uno a uno porque además

en este parlamento hace algunos meses es decir para nosotros

por otro eléctrico así sin más sino que se trata también de reducir la cantidad de coches que circulan por nuestras ciudades y paralelamente transitar hacia un modelo en el que esos vehículos que sí que tendrán que transitar sean efectivamente eléctricos

que pensamos que ha quedado sobradamente constatado en experiencias en otros países

es que el modelo de cheque de dinero público para la compra de vehículos eléctricos es una política económica pues regresiva y clasista en estos momentos

con las condiciones desde luego que hay hoy en día son quienes se lo pueden permitir quienes van a poder acceder a ese coche eléctrico gracias a este tipo de ayudas es decir subvencionar esta compra

pueda acceder a este tipo de vehículos eléctricos simplemente

eso es lo que hemos visto en las experiencias más recientes y pensamos que ese sería el efecto de lo que ustedes proponen ahora mismo en este momento por eso nosotros nuestra enmienda la enmienda que hemos presentado a la totalidad va en línea con otras iniciativas que hemos traído a este pleno

que se debe abrir ya un debate en profundidad en relación a los sectores que ya sean por cambios socioeconómicos como podría ser el aeronáutico

el sector de la automoción deben reorientarse a sectores de actividad compatibles con esos cambios precisamente para garantizar el futuro de la industria y de los puestos de trabajo

y sobre todo el saber hacer de sus trabajadoras y trabajadores especializados en sectores de alto valor añadido

son un valor de país en sí mismo y las instituciones públicas los deben defender y junto a las plantillas iniciar un proceso de reorientación y de planificación eso mismo creemos y hemos defendido siempre para otros subsectores para empresas de las que hemos

la naval tubacex y lo mismo se puede aplicar en este sector para una empresa como mercedes que tanta importancia tiene aquí al lado en gasteiz nosotros pensamos que cuidar la industria de la automoción es muy importante

es privada no han hecho los deberes pensamos que se debe impulsar la industria pero las ayudas deben encaminarse a dirigirlas hacia nichos de mercados que ahonden en la crisis ecológica en la que vivimos

creemos que ha llegado el momento de descartar definitivamente el gasto de dinero público para incentivar la compra de vehículos

y que además van en contra de los acuerdos de parís

el gobierno vasco en dos mil diecinueve porque si no ese tipo de declaraciones

los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos es tan escueta y generalista que podría servir para una cosa y para la contraria luego este tipo de cosas pues sirven para hablar de desarrollo sostenible y a la vez insistir en aprobar partidas para pozos de gas nosotros pensamos que se debe empezar a trabajar en serio hacia la electrificación con el objetivo de la descarbonización del sector automovilístico planificar organizar cuál debe ser el futuro para garantizar

y no repetir simplemente viejas recetas que además traen otro tipo de problemas por lo tanto nosotros no vamos a apoyar su iniciativa

sí quisiera decirle que pensamos sinceramente que su iniciativa

la importancia de la electrificación de determinados parques de vehículos nosotros no la compartimos por las razones que de alguna

le he explicado si transformamos coche diesel coche gasolina por coche eléctrico en proporción uno a uno

y por lo tanto pensamos que hay que buscar otro tipo de soluciones y planteamos otro tipo de soluciones pensamos que ese tipo de planteamientos son

conociendo durante muchos años y que nos van a llevar a callejones sin salida en cuanto a cambio climático y en cuanto también a la propia industria y en lo que a nosotros nos importa

es el empleo de calidad que pueda generar ese tipo

baina kotxe elektrikoekin bakarrik egiten badira ematen badira es verdad que la situación es muy complicada en el mercado de la automoción el señor gil ha mencionado algunas de las razones por las que no se venden coches o ha bajado dramáticamente la venta de coches evidentemente como estamos en euskal herria voy a mencionar una frase de un vasco y como hablamos de coches una frase henry ford

evidentemente no son tiempos para hacer ese tipo de inversiones

un hecho henry ford se dio cuenta de que podía fabricar tantos coches como implementó la fabricación en cadena que necesitaba compradores compradores que tuvieran el poder adquisitivo suficiente para comprar sus coches y entre otras cosas un día de enero

dobló el salario a sus empresarios por tanto a las derechas de este país

cualquier otro tipo de bien de consumo evidentemente está muy deteriorado precisamente por años de políticas que han atacado los salarios han atacado la estabilidad en empleo

plan integral de movilidad eléctrica un plan que habla de que tenemos una misión y una visión tal y como se estila en el mundo empresarial y la visión dice euskadi

a las necesidades de sus habitantes convirtiéndose en un territorio líder en el uso de medios de transporte eléctricos y en un referente internacional indispensable del conocimiento y la industria vinculada a la movilidad eléctrica esto más que una visión a día de hoy desgraciadamente

o es una visión chamánica producto de haber ingerido pelyote porque nada más lejos de la realidad no solo no estamos avanzando al ritmo previsto

en la electrificación del transporte la patronal de la

que mide el grado de desarrollo de la electrificación del transporte particular y desde luego ustedes no lo verán pero comprobarán que aquí

entre las comunidades del estado si la media está aquí el país vasco está por debajo de la media y lo que es peor el estado español está muy por debajo de la media europea

se vuelve a repetir el resultado la media del estado español el país vasco

por tanto estamos a la cola de la cola y en un indicador combinado de electromovilidad

país vasco unión europea estado español por tanto en estos momentos estamos a la cola de la cola de la implementación del coche eléctrico en europa

que tiene que ser resuelto entre otros por esta administración alemania y francia ya han excluido de sus planes renove y de apoyo a la compra de vehículos a todos aquellos

un eléctrico reduce las emisiones sustituir un térmico viejo por un eléctrico hasta tres veces más que sustituir un térmico viejo por un térmico nuevo las marcas además son ya conscientes y se está hablando ya

que viene la euro siete que el fin de lo térmico es algo inminente que el fin de los motores tradicionales es algo inminente el mejor favor el único favor que le podemos

también es mandarles el mensaje de que se apunten lo antes posible o incrementen los esfuerzos que están haciendo en la transición hacia lo eléctrico porque no habrá otro futuro en la automoción que la electrificación y el que no sea parte de ese futuro no será parte

gracias presidenta egun on los socialistas vascos queremos encuadrar este debate

político de potenciar la movilidad sostenible en euskadi conectada con los principales retos que estamos afrontando de forma global como son la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la innovación y la digitalización la comisión europea en el ámbito de la automoción

fijar mecanismos de financiación europeos para el desarrollo de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico la renovación de flotas por vehículos eléctricos por parte de municipios y empresas

a una movilidad más limpia la comisión europea también está indicando y eso es muy importante que la inversión pública para relanzar la recuperación del sector de la automoción debe ir asociada al compromiso de la industria de invertir en movilidad más limpia y sostenible esta estrategia

de ahí que el gobierno de españa en su plan de recuperación transformación y resiliencia plantee destinar una parte de los recursos

la modernización la descarbonización y digitalización de nuestro sector de la automoción a finales del año pasado el ministerio de transición ecológica y reto demográfico

relativa a la movilidad eléctrica sobre infraestructura de recarga innovación y electrificación del parque móvil y euskadi ha presentado

y otro proyecto de gigafactoría con baterías de nueva generación

las prioridades de reforma e inversión en las diversas áreas de las políticas públicas con el objetivo

uno de esos ocho componentes el cuarto concretamente es el de la movilidad sostenible hoy el debate que se plantea respecto al ámbito comercial y de venta de vehículos

de valor de la automoción el análisis de lo ocurrido en dos mil veinte con los concesionarios de vehículos vascos nos indica que se han visto reducidos sus ingresos en un diecisiete por ciento y que la caída de ventas se ha cifrado en un veinticuatro por ciento si analizamos los datos y nos basamos en la facturación el área que más sufrió fue la del vehículo nuevo cayó un dieciocho por ciento hasta los mil sesenta y tres millónes de euros

se movieron ciento cuarenta y cinco millónes de euros en esta situación

en un instrumento esencial para el mantenimiento de las plantillas y por tanto también para que el mercado de la automoción pueda remontar de los datos publicados

según por comunidades autónomas en el mes de enero de dos mil veintiuno en euskadi se produjeron mil setecientos veinticuatro matriculaciones que supone una cuota del cuatro coma uno por ciento

del año dos mil veinte en el ranking por comunidades autónomas euskadi es la sexta comunidad en cuanto a unidades de vehículos matriculados por cuota es la quinta

que menos descenso de matriculaciones ha tenido en enero de dos mil veintiuno las razones que han ocasionado esta caída de ventas de vehículos en enero y febrero en el conjunto de españa según expresan entidades como faconauto anfac o gamvam en algunos medios de comunicación además son diversas

en el mes de diciembre de dos mil veinte se realizaron muchas automatriculaciones por el cambio de impuesto de matriculación con motivo de la aplicación de la normativa de emisiones

los concesionarios compraron muchos coches para ampliar los objetivos de las marcas si bien esos vehículos

y al tener que darle salida se impide la matriculación de nuevos vehículos

ante la incertidumbre por la covid diecinueve y la llegada de la electrificación están retrasando todo lo posible la compra de un vehículo nuevo y tampoco hay que olvidar que el turismo un sector que ahora mismo está de capa caída desde el comienzo de la pandemia promueve la matriculación de cerca del treinta por ciento de los vehículos en españa por parte de las empresas alquiladoras otra de las razones que se esgrimen es que en enero de dos mil veinte

no había comenzado por tanto se desvirtúa la referencia comparativa además en el mes de enero de este año se ha contado con dos días laborables menos con cinco fines de semana completos y en dos mil veinte sin embargo hubo cuatro fines de semana completos y esto repercute de forma negativa

también la paralización de actividades en medio país por los efectos de aquella borrasca la llamada filomena en el ámbito de las ventas tuvo su repercusión e hizo que cayese el incentivo de ventas en vigor del impuesto de matriculación también fueron objeto o mejor dicho fueron efecto de esas caídas los datos en cuanto a los canales de compra son también

el canal que mayor caída ha experimentado ha sido el de las alquiladoras

el de los particulares cayó un cuarenta y tres coma ocho por ciento y el mejor canal de compra ha sido el de las empresas con una caída del dieciocho coma siete por ciento

el segundo tipo de combustible que mejor comportamiento ha tenido en el mes de febrero de este año los híbridos con un crecimiento del diez por ciento la gasolina y diesel

los eléctricos han caído un cuarenta y dos por ciento y el gas cae un veinte por ciento el único segmento de venta que crece en febrero son los vehículos de más de veinte años lo que impide

y la necesaria renovación del parque para cumplir con los objetivos de descarbonización que se logra con la dinamización de este mercado

en varios frentes trazar una estrategia de reactivación económica y del empleo global con políticas y líneas de actuación bien definidas también en el ámbito de la automoción

las acciones y líneas de actuación del gobierno vasco respecto a los ecosistemas industriales entre los que se encuentra la automoción

que supone dos tercios de la actividad industrial en euskadi el diecisiete por ciento del pib vasco sin contar con la planta de mercedes

en cuanto a la dinamización del mercado han sido varios los programas públicos que se han implantado en españa y en euskadi las ayudas que hemos tenido en euskadi para comprar vehículos en dos mil veinte han sido el plan moves el plan renove dos mil veinte ambos de ámbito nacional

dos mil veinte un programa de ayudas propio a inversiones de transporte y movilidad eficiente y también con el plan pavea dos mil veinte un programa de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos en euskadi gestionado por el ente vasco de la energía y que ha contado con un crédito de diez millónes de euros los socialistas vascos hemos presentado una enmienda conjunta con el grupo nacionalistas vascos

las ayudas públicas necesarias con el objetivo de favorecer la recuperación económica y la transición energética así como luchar contra el cambio climático en el ámbito de la movilidad la acción del gobierno vasco se establece tras el análisis y evaluación de la repercusión de los programas que se han puesto en marcha

y las transformaciones que la industria de la automoción y el ámbito de la movilidad van a experimentar a corto y a medio plazo de ahí que el compromiso del gobierno de poner en marcha políticas de ayudas

siguiendo las líneas estratégicas establecidas por el departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente

en la que participa el gobierno de españa y las comunidades autónomas además de toda la cadena de valor del sector del automóvil desarrollando además el plan de impulso

deben ser opciones que den respuesta por su puesto en contacto con el sector al problema que estamos hoy debatiendo gracias

eguerdi on bueno yo voy a comenzar señor gil diciendo que al gobierno vasco le gustan los planes renove y esto no es una conclusión que haya sacado yo

de las ayudas puestas en marcha por el ente vasco de la energía pues es notorio de hecho el año pasado se inició un plan renove el treinta de enero

se le duplicó la asignación es decir dos meses después

se duplicó la asignación y es un plan renove que el año pasado ha funcionado muy bien tanto es así que antes de su fecha de finalización que era enero de este año

estaban esos diez millónes de euros del plan adjudicados a los compradores claro habrá planes renove en el futuro pues probablemente sí eh sí vemos que al gobierno los años anteriores le gustan los planes renove y

planes renove pero sabemos que no podemos especular con este tipo de cosas porque sabemos que si se anuncia de alguna forma

es que en los concesionarios no llama nadie para comprar llaman para preguntar entonces no hay que hacer ningún tipo

de expectativa y tampoco se puede hacer público por parte del gobierno ningún tipo de calendario ni ningún tipo de frecuencia que indique

conseguiríamos eso mismo un mercado absolutamente cautivo un mercado absolutamente dependiente de las ayudas del gobierno y no es eso lo que los concesionarios en primer término quieren

el análisis se hace a principios de año el gobierno hará su análisis y decidirá lo que tenga que decir pero no es labor al menos de este grupo

sobre ese tipo de cuestiones y la segunda vertiente del debate a mí

interesante y es más más polémica y además me ha gustado ver los distintos matices que introducían en el debate

a quién ayudamos en los planes renove o dicho de otra forma tenemos que arrinconar las tecnologías hoy tenemos que arrinconar las tecnologías de diesel y gasolina pues nuestra postura en este sentido es clara no podemos a día de hoy arrinconar el diesel

la construcción del coche eléctrico la huella ecológica que deja el coche la construcción del coche eléctrico y de su batería a día de hoy de verde no tiene nada

es más contaminante que la de un diesel o la de la gasolina y además el

en las electrolineras tampoco es verde bien me dirá usted pues avancen ustedes en esa materia evidentemente hay que avanzar señor casanova en esa materia ahora espero que les venga bien porque en el pts la semana pasada ya vimos que las eólicas no le vienen en ningún lugar en todo caso hay que avanzar ahí pero la realidad que tenemos hoy en día es el que hay la segunda es que

y bueno es un gran trasatlántico que está virando hay una gran transformación además

y la transformación en el modelo energético también en el sector de la automoción es

a planes agigantados no hay más que ver los planes de inversión de volkswagen de toyota anunciados hace escasamente mes y medio y por tanto es algo que está avanzando

pero a día de hoy aún sigue habiendo personas que viven del diesel y de la gasolina que hasta bien poco ha sido el punto fuerte de europa el punto fuerte de europa y

yo digamos que vi perplejo

dieselgate alentada posiblemente por otros países que a lo mejor lo que hacen bien es tecnología híbrida

no hay que ponerles a día de hoy ningún tipo de estigma y

el diesel o la gasolina es pensar quién es el beneficiario último de los planes renove y a mí señor casanova su enmienda me parece clasista la verdad es que coincido con el señor hernández por qué vamos a ver del plan renove se benefician habitualmente personas que exprimen su coche durante diez o quince años hasta que el coche vale menos de tres mil euros que es más o menos o dos mil que es más o menos

no estamos hablando de clases altas que cambian su bmw cada cinco años

que se compra por cierto el año pasado el coche más vendido que se compra un dacia duster en primer lugar en segundo lugar un seat león

y por tanto no podemos ahora abocar a todos los consumidores

yo creo que en fin en esa lucha continua en esa compartimentación que tiene la izquierda de causas yo creo que a veces no se os tiene que olvidar que hay que defender al currela en fin los árboles de amazonas también nos preocupan muchísimo de verdad no lo digo

pero uno no tiene que perder el norte no podemos a día de hoy implementar las ayudas renove solamente en los coches eléctricos

de hoy posiblemente la realidad dentro de cinco años sí cuando ya haya ocho gigafactorías de baterías en europa cuando ya

tengamos más electrolineras y la gente ya tenga en su garaje a un costo un poquito más normal

su coche por tanto ese punto de inflexión se va a dar y se va a dar

que son políticas muy exigentes y que son prácticamente de planificación central

en fin soy sector privado bien hay libertad de mercado en europa también

y produce como quiera pero ven tu margen de producción es este vía emisiones

que no sale rentable incumplir la norma por tanto europa acertadamente lo que está haciendo es que europa se ponga como punta de lanza como pionera en esa transformación hacia lo eléctrico

en el coche eléctrico del mundo con muchísima diferencia

pero yo estoy seguro conociendo el carácter alemán que posiblemente haya sido muy inducido

normativas de emisiones que son increíblemente exigentes el señor casanova mencionaba el euro seis el euro siete que viene que probablemente se aprobará

para dos mil veinticinco el euro siete va a marcar probablemente un máximo de diez miligramos por kilómetro en los coches diesel ni volkswagen polo de dos mil once tiene setenta caballos era un coche con muy poca potencia

a diez en un lapso de tiempo de diez años es decir estamos

muy ambiciosa por parte de europa y que busca eso precisamente ese punto de inflexión en el cual los coches eléctricos resulten atractivos por lo que ofrecen y por su precio no por las ayudas públicas que reciben y eso se está dando y posiblemente

de una forma más natural por tanto la guerra no es eléctricos versus gasolina sino coches antiguos

porque lo ideal sí sería que todos comprásemos coches eléctricos pero en fin yo me pregunto aquel que se compra un dacia duster o un seat león

tiene la capacidad económica el poder adquisitivo de comprarse hoy un volkswagen idhiru pues yo creo que no la mayoría al menos no hay que tener en cuenta la realidad del momento beraz eta bukatzeko gure europak mugikortasunaren eremuan

una capacidad para la aplicación florida del epíteto que me ha dejado sorprendido pero le agradezco porque me resulta muy divertido a estas horas de la tarde si para usted un plan renove

entonces no sé cómo llamaría usted a la propuesta que aparece en su enmienda

especialmente dice las susceptibles de entrar en crisis es decir las menos competitivas

garantizar la continuidad de ninguna empresa que no sea competitiva y menos utilizando para ello el dinero de todos los ciudadanos montar una empresa me estoy yendo un poquito del tema pero enseguida vuelvo montar una empresa

por la que nacen crecen y mueren claro que también se puede dedicar el gobierno vasco

a comprar empresas en crisis y así además de hacer un gran favor a sus dueños estatalizamos la economía cosa que ya no se hace ni en las pocas dictaduras comunistas que quedan en el mundo rusia china vietnam cuba venezuela etcétera yo le recomiendo al señor hernández que actualice su manual

y por el medio ambiente mire proponer un plan renove no es nada liberal es todo lo contrario es justamente

está justamente en el otro extremo no y desde luego

esto es justamente para ayudar a la gente que no puede para ayudar a la gente que lo necesita y vale ya me queda claro que usted va a votar que no a nuestra pnl lo que no me queda claro es si usted

señor casanova estamos de acuerdo en que estamos a la cola de la introducción del coche eléctrico y de ahí se debería deducir que sí a un plan renove entiendo y si estamos todos de acuerdo en que hace falta acelerar la electrificación del sector

de ventas importantes y además al gobierno vasco le gustan los planes renove

pues entonces entiendo que la conclusión lógica es que adelante

de hacerlo se tratar de hacerlo y hacerlo pronto y hacerlo rápido y hacerlo ahora que es cuando hace falta

por eso le proponemos hacerlo ahora no estamos de acuerdo

hacia la electrificación y claro efectivamente también nosotros consideramos que no se puede todavía arrinconar

porque efectivamente se trata de ayudar a que se puedan cambiar los coches

son muy caros y no podemos condenar a que la gente que no quiera comprar coches eléctricos no tenga ayudas

señor gil vegas de su intervención se deduce que

a comprar un coche es el tipo de actividad política que tiene que hacer que tienen que hacer las administraciones públicas para ayudar a los que más

que no llega a fin de mes lo que necesita es que les ayudemos a comprar un coche sí usted ha llevado un poco al extremo porque ha querido

cuando hablamos entre usted y yo o cuando debatimos entre usted y yo usted procura acabar hablando del comunismo y de las dictaduras comunistas porque desde luego

he descrito sí un modelo que nosotros consideramos con una serie de políticas que se han venido aplicando en los países que sí consideramos liberal que es una descripción ideológica de un modelo concreto mire usted plan renove sí o plan renove no nos hace usted la pregunta directa porque no le queda claro

los planes renove en el futuro no pueden ser como los planes renove hasta ahora como los planes renove que ustedes proponen y por ejemplo voy a ir a la cuestión concreta que usted está de la que ustedes han venido aquí hoy a proponer una iniciativa concreta parque de vehículos eléctricos

los planes renove para nosotros tienen que

a potenciar el transporte público es decir disminuir el fomento de la compra del coche privado aun eléctrico y ayudar a la industria a encaminarse a la producción por ejemplo de autobuses

de vehículos colectivos de corte eléctrico por darle la respuesta concreta a la pregunta que usted

siguen insistiendo en los vehículos de combustión y en ayudar a través de dinero público a que se mantengan los vehículos de combustión

y nosotros lo que venimos a decirles es que plan renove sí o plan renove no para nosotros detrás de lo que hay detrás del plan renove es algo mucho más complejo y

mirando en el corto plazo porque lo que tenemos detrás en este caso es

que en euskadi es muy importante para el empleo de miles de personas y porque tenemos

encima de la mesa podemos tener un futuro con más o menos coches con más o menos empleos si no tenemos planeta mire que yo soy el menos verde de mi coalición si no tenemos planeta no vamos a tener ni lo uno ni lo otro y nosotros por eso pensamos que el camino debe ser cambiar el modelo de transporte no podemos ir a un futuro

el actual parque de coches de combustión que hay en el mundo se transforme simplemente por un parque de coches eléctricos hay que cambiar también el modelo y los planes renove tienen que ir también en esa dirección y pensamos que se debe fomentar la reorientación de la industria del automóvil

para que ayude también al cambio de modelo de movilidad que es muy importante en ese sentido por eso nosotros no estamos de acuerdo con su iniciativa y se lo digo claramente para nosotros que simplemente responderle a plan renove sí o plan renove no porque para nosotros detrás de este asunto es muy importante la planificación

de planificación centralista etcétera y que de alguna manera europa obligaba

a esa planificación a través de una serie de parámetros y obligaciones eso es cierto bueno a mí me falta la parte de la propiedad que sigo pensando que la propiedad social pública y de los trabajadores es el mejor camino pero los planes renove

y por eso yo les hablo les hemos hablado de políticas liberales porque son las que han venido aplicando y es simplemente dinero público para que las personas compren eso es el plan renove que ustedes siguen planteando y sin descartar

ez bozkatuko dugu la propuesta del partido popular nos parece un caballo de troya incluso

pero en el fondo en un envoltorio de apoyo a la movilidad eléctrica a las familias a los autónomos y demás

algo que no podemos asumir para nosotros la financiación de la adquisición de vehículos privados no debería ser nunca nunca una tarea de la administración pública nunca se debería invertir en otro tipo de políticas de movilidad compartidas

estamos en un momento oficialmente de emergencia climática y cada año ganado en la lucha por la electrificación del transporte particular son toneladas

en situaciones de excepción se aplican políticas de excepción y en este caso en ese ámbito de la excepcionalidad es

que se pueda subvencionar con un objetivo muy concreto la adquisición de un tipo de vehículos muy concretos y no solo con la finalidad de beneficiar a las personas que reciban esa ayuda sino

al que hemos hecho alusión de las economías de escala para que el conjunto de la sociedad

vehículos la propuesta de podemos la vamos a respaldar

a las políticas de apoyo o no apoyo a la compra de vehículos y por eso hemos centrado más en cómo deberíamos o cómo entendemos que se deberían definir esas políticas

su enmienda y su intervención ha sido no sé cómo definirla ya evanescente porque es que lo que ustedes han propuesto

sabemos más o menos a qué se refiere pero ahí no sabemos si están hablando de diez millónes para un plan renove nuevo como el año pasado

la aplicación proporciona de los ocho mil millónes que ha invertido francia no sabemos

es necesario yo creo concretar señor arruabarrena no haga demagogia

un coche viejo y todos los patinetes que estamos viendo por las calles patinetes eléctricos con gente talludita encima no son solo por hobby por esnobismo

les margina es clasista pagar un plan renove para el que pueda adquirir un coche dejando fuera a esa gente es clasista por ejemplo a la agricultura ecológica

vamos a ser precisos con los términos el coche más vendido si no se equivoca es un dacia pero no el duster sino el sandero que es todavía más pequeño y más barato y acaba de tener su primera versión eléctrica el sprint

por lo tanto ya estamos hablando de unos términos asumibles el coste medio del coche

por tanto por tanto usted hablaba del i de tres de

con unas ayudas que compensara a esa parte se acercaría de hecho en alemania con los nueve mil euros de ayuda el i de tres se queda en veintipocos mil euros y eso para el poder adquisitivo

en situación de dificultad que no puede acceder a ese ni a otro vehículo pero es un coste asumible para la clase media en general

se van a abaratar y va a ser algo radical y lo vamos a ver en los próximos años pero hay que darle un empujoncito porque decía que aquí los días los meses los años se miden

en grados de calentamiento y no estamos para perder el tiempo no hemos querido hablar de política industrial pero es evidente que tenemos encima un reto fundamental en cómo desarrollar toda la transición porque al final la industria vasca no depende de los coches que compremos aquí dependen de las decisiones de compra que se tomen en el resto porque es una economía que exporta

de la industria automotriz europea y alemania y francia han excluido de sus planes de apoyo a la compra de vehículos a los vehículos que no sean eléctricos por qué porque mandan un mensaje a la industria de la automoción

o sois los mejores haciendo coches eléctricos o no vais a estar y eso es ayudar a la industria

la pelea por la fábrica de la gigafactoría que necesitamos implantar en este país con fondos europeoso sin fondos europeos nos están adelantando

aquí nos estamos jugando mucho también y necesitamos desde una perspectiva industrial para poder seguir desempeñando el papel que venimos desempeñando hasta ahora en el contexto global de la automoción

de la presidencia y desde el escaño tan solo unas notas

no ha inventado nada el grupo populares vascos y ciudadanos

con esta iniciativa y creo que además ha quedado patente que aquí hay que hilar

sus posiciones y aquí no se ha presentado ninguna enmienda transaccional ante esta cuestión eso también significa algo y creo

mire los socialistas vascos conocemos las bondades de los planes renove desde hace mucho tiempo en el año dos mil nueve con el gobierno del lehendakari patxi lópez

los planes renove tuvieron digamos la posibilidad de estimular e incentivar el consumo en unos momentos francamente crudos como le digo ante una situación financiera y económica que no había tenido parangón desde hacía

pero siendo este un instrumento importante

la necesidad de que haya ayudas públicas y ayudas públicas sí

toda la cadena de valor del sector de la automoción algunos

ya lo han explicado no solamente vale con el hecho de ayudar a lo que es el mercado la venta la compra

eficientes limpios y adecuados a la capacidad económica de la media de las personas

por lo tanto creo que lo importante es tener como objetivo la renovación de ese parque de vehículos hay que incentivar ese consumo y tenemos que lograr que haya un parque de vehículos eficientes y limpios en emisiones usted hablaba de los autónomos y pymes mire en los planes moves renove

a los autónomos y a las pymes no se dejaba no se han excluido en ningún momento daba la impresión por su iniciativa de que sí había sido cuando no ha tenido lugar este hecho pero también es verdad que usted plantea condicionantes que no tienen por qué en estos momentos definirse ni constreñir

líneas de ayudas públicas al sector de la automoción y efectivamente le decía antes algo pasará cuando no hemos logrado que haya ninguna enmienda de transacción por lo tanto visiones diferentes visiones particulares que no han tenido digamos el beneplácito de toda la cámara o de la mayoría de la cámara la enmienda

izquierda unida decía lo mismo sirve para una cosa que para otra

pero tiene esa virtualidad y esa bondad que de hecho se plantean ayudas públicas y con una serie digamos de objetivos que es la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático por lo tanto hay una definición y hay una estrategia

decirle al señor casanova que los socialistas vascos ya lo he comentado antes en mi primera intervención cuando el gobierno vasco se presenta a dos manifestaciones de interés

de la gigafactoría y la cuestión de las baterías de nueva generación

ese paso no se podía olvidar y creo que si euskadi está ahí es un buen hecho y es un buen paso por lo demás nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera

solicítenlos en los gobiernos donde estaban porque en euskadi están pidiendo el segundo el año pasado ya

al doble de su dotación y aquí están pidiendo otro tres meses después de que terminara

en distintos gobiernos señor hernández yo estoy de acuerdo con que hay que cambiar el modelo de movilidad y el modelo de movilidad está cambiando está cambiando de raíz

lugar del esquema de coche de propiedad vamos a un coche como servicio está la electrificación está el hidrógeno está el mix de combustibles que están investigando en petronor está la economía circular hay un montón de cambios de paradigmas ahí y están cambiando

una semilla en esa joya que tienen en boroa junto con

esperemos que germine en proyectos interesantes pero desde luego serán aportaciones a un cambio que ya se está dando en este tipo de debates hay a veces

donde bildu y podemos con sus matices y sus diferencias caen en paradojas un poco esquizofrénicas porque es como

dice usted señor casanova el plan renove tal y como está confeccionado

donde no se arrincona al diesel y la gasolina estáis poniendo una barrera de entrada a los que no se pueden comprar el coche pero es que usted le suma dos barreras más

y luego que hay que tener un garaje en propiedad hoy en día con la tecnología y porque nadie va a estar

mirando al cielo o tomándose un café entonces realismo a día de hoy

y conforme vaya generándose esa masa crítica a la que también usted ha hecho referencia y dónde se hará esa masa crítica pues donde los ciudadanos tengan un poder adquisitivo inmensamente mayor que

por ejemplo en noruega usted ha mostrado una gráfica muy interesante no he podido ver pero creo que en la primera posición esta noruega

el audi tt e tron el segundo el tesla model tres y el tercero el volkswagen idhiru y usted me dice bueno es que viene ahora

con un precio de quince mil euros bueno yo he escuchado dieciocho mil pero en todo caso bien será económico

con autonomía de doscientos kilómetros entonces esto no va solamente de concienciar esto va

de hacer una oferta atractiva y para eso la estrategia de europa y la estrategia de este gobierno pues es acertada es apretar mediante regulaciones de emisiones para que los fabricantes se pongan y se sigan poniendo porque se han puesto muchísimo las pilas

traigan al mercado ofertas que sean interesantes ya digo no por la cantidad de subvenciones que reciban sino por sí mismas por su atractivo por su precio y por sus prestaciones